hay un cierto consenso ya de que todas las alarmas están sonando la comunidad científica

meteorólogos físicos biólogos ya no saben ni cómo explicarlo se habla de cambio climático como síntoma se habla de la pérdida dramática de

extinciones masivas la alarma y los titulares están asumidos por casi todo el mundo y estos dos últimos días hemos podido ver

también del congreso alrededor del cambio climático de change the change pues ha habido muchas noticias

el calentamiento global es un síntoma de la insostenibilidad de nuestro planeta la falta de agua potable puede ser un serio problema titulares de esta misma semana en la que se nos habla que en el estado la temperatura media de las ciudades subió

noticias que nos hablan de la contaminación del aire provoca el doble de muertes según un informe de esta semana de lo que se había estimado hasta ahora

diciéndonos que se han retrasado las medidas en la lucha contra el cambio climático y los plazos nos han estallado

baina beno piska bat lau kontu aipatzearren el estado general del medio ambiente ha seguido deteriorándose

la incapacidad constante para dotar medidas urgentes está teniendo repercusiones negativas sostenidas y potencialmente irreversibles sobre los recursos ambientales esenciales y la salud humana los avances son demasiado lentos para alcanzar las metas incluso progresan en sentido equivocado eta niri deigarriena

para detener y revertir esta situación y proteger así la salud humana y ambiental iruditzen zaigu hori dela markoa markoa latza dela

pocas dudas hay a esas alturas de que el siglo veintiuno será la prueba

y es normal también que sea esta generación que está creciendo ahora que tiene alrededor de quince años que sea la que nos mire y la que nos mire con un cierto resentimiento porque cuando planteamos los horizontes de cambio climático

con las políticas que llevamos actualmente vamos a llegar al año dos mil cien con un calentamiento entre cuatro y seis grados que va a ser completamente catastrófico claro el dos mil cien a nuestra generación se nos empieza a quedar lejos

el dos mil cien lo plantean también como un horizonte de vida y si no es el de ellos es el de sus hijos y sus hijas eta zentzu horretan nik uste dut

ez dela ari funtzionatzen cada vez tienen más claro que algo no cuadra porque

hablar todo el día de sostenibilidad aparentemente todo lo que hacemos es sostenible

tan sostenible como creemos que somos y las políticas que hacemos no deben ser y de hecho me ha llamado la atención una de las mayores reivindicaciones o sea una

egia esan porque tiene la sensación de que no estamos diciendo la verdad

parlamento insta al gobierno a que impulse los trabajos para alcanzar un pacto vasco de la energía

en los términos en que se detallan la verdad que hemos detallado bastante hay un montón de especificaciones que

pero sí que es verdad que hemos querido ser celosos y cuando hemos negociado hemos querido establecer bien los términos para que se hagan esos trabajos

por detrás un objetivo que es técnico

para el año dos mil cincuenta la economía vasca tiene que ser una economía neutra en emisiones de carbono como cuestión ineludible

empezar a hacer el camino hacia atrás es decir hasta el día de hoy para ver qué

para llegar a ese escenario para ello lo que se propone en esta propuesta que parece que va a ser aprobada por una amplia amplísima diría mayoría lo que se propone es que se cree la comisión de una serie de personas expertas

y a partir de ahí se les dé un plazo para elaborar un documento un documento que se llame el pacto vasco por la energía que se realizará durante ese año

viendo las mejores técnicas y la mejor ciencia disponible

pasando inevitablemente por ese dos mil treinta y esos objetivos europeos como mínimo para llegar a dos mil cincuenta con los objetivos que nos hemos marcado

hortxe dago hor dago mamia norantz joan behar dugu el debate ya no es si necesitamos hacer una transición energética es

el debate ya no es si necesitamos o no las energías limpias tenemos que abandonar las energías fósiles cuanto antes el debate no es

las energías renovables son más baratas que la mayor parte de las fósiles y también que la nuclear y en menos de diez años han bajado sus precios un ochenta por ciento el debate hoy en día ya no es si tenemos que cambiar la estrategia energética vasca que se ha quedado desfasada

el debate es qué modelo energético vamos a desarrollar en este país si nos vamos a quedar con el modelo actual o vamos a ir a otro modelo y ese otro modelo qué modelo será que tenemos que movernos

la cuestión es hacia dónde tenemos que movernos tenemos un modelo energético actual que es ineficiente que es caro y no hablaré aquí

de cómo tenemos una energía que es inasumiblemente cara para nuestras

pero además nuestro modelo es injusto es injusto porque en dos mil quince uno puede ir a los periódicos y encontrarse dos noticias radicalmente diferentes doscientos treinta y siete mil vascos pasan frio en sus hogares por la pobreza energética

en el mismo año en el mismo año pobreza energética para la gente de la calle riqueza cada vez mayor para las empresas

del oligopolio y este sistema injusto crea descontento crea rabia crea conflicto y lo estamos viendo en las calles de algunos países ya los chalecos amarillos no son una casualidad cuando un sistema es injusto genera protestas y cuando además además el sistema es porque este treinta y uno de diciembre pasado más de doscientos mil personas en este país en españa se han quedado sin el bono

gracias al acuerdo de los partidos mayoritarios

que este modelo es insostenible pero si vamos a replicar este modelo con energías renovables no estamos haciendo nada y esta es la cuestión que tenemos que traer que estamos obligados nuestro grupo a traer hoy aquí

modelo energético que necesita euskadi tiene que ser sostenible y basado en las energías renovables es cierto

apoyo a la ley de sostenibilidad energética pero tiene que ser también justo y democrático porque si no lo es si no ponemos la energía

sino producimos la energía de forma descentralizada y cerca de los puntos de consumo estaremos replicando un modelo que tarde o temprano nos va a volver a estallar en las manos

y democrático el modelo que en alemania está siendo el éxito no solamente de las energías renovables sino

asumibles tanto para las familias como para las empresas el modelo alemán lo voy a poner aquí pone las energías renovables en manos de la ciudadanía la mitad de la producción de la energía renovable en alemania está en las familias

y otro quince por ciento y otro quince por ciento está en manos de los ayuntamientos y otro diez por ciento está en manos de las propias empresas y otro diez por ciento de los agricultores y agricultoras es decir la energía en alemania no es de unos pocos de todos y de todas y este es el sistema hacia el que tiene que ir euskadi y nuestra duda es si en este camino hacia la transición que hoy se va a emprender

va a ir este país nuestro grupo tiene claro cuál es nuestro modelo lo que no tenemos claro es cuál es el modelo del gobierno cuál es el compromiso del gobierno y voy a poner un ejemplo muy sencillo que ha sucedido hacía varias semanas el lehendakari y

una gran planta fotovoltaica solar en el sur de álava situada lejos de todos los puntos de consumo centralizada y en manos de las empresas de siempre vemos que empresas las soportan y son las de siempre petronor sener

de siempre y al mismo tiempo que se presenta como un éxito esa gran planta solar centralizada nuestro grupo pregunta sobre qué sucede con los paneles solares térmicos que tenemos en todas nuestras casas y el gobierno nos dice que el ochenta y cinco por ciento de esos paneles no

paneles descentralizados paneles en manos de las personas para abaratar la energía de las personas esos no funcionan los que sí funcionan son

a las mismas empresas de siempre por eso nuestra duda por eso nuestra duda a día de hoy es cuál va a ser el compromiso real del gobierno vasco porque el compromiso del proponente del señor otero yo lo tengo claro le nombraría consejero

sin ninguna duda sin ninguna duda pero me gustaría saber cuál es el compromiso real de los grupos que soportan al gobierno

con la transición energética y con el negocio que va a suponer esa transición energética si ese negocio va a quedar en manos de las mismas empresas de siempre o si va

un comité de personas expertas para pilotar la transición energética nuestra duda es cómo van a desarrollar su trabajo porque tenemos un ejemplo muy reciente en el congreso de los diputados de un comité muy similar que ha fracasado que ha fracasado y ha sido un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas y de cómo un gobierno cuando quiere puede manejar a un comité de personas expertas para conseguir los objetivos que quiere

en su momento al partido popular ese comité de personas expertas que se creó en el congreso de los diputados hizo un dictamen un dictamen con mucha información un dictamen con todos los datos técnicos del mundo pero con pocas propuestas y débiles con algún voto particular y con un único resultado

y después gloria por lo tanto si no hay una voluntad política real y hasta ahora no la ha habido de cambiar las políticas

va a tener lo que ha tenido el comité de expertos de autogobierno y tenemos ese ejemplo muy reciente aquí en este parlamento lo que no es capaz de resolver

se le pasa a un comité de expertos para que sean ellos quienes trabajen los disensos y así no se puede hacer nada así no se puede hacer nada nosotros lo que pedimos hoy

es que se muestre la voluntad política real de todos los grupos de avanzar hacia una transición más sostenible pero también más justa y más democrática gracias

gracias señora presidenta señor lehendakari señores consejeros señorías

para la transición energética y tenemos los análisis y las propuestas de esa comisión de expertos aquí están

propuestas para la descarbonización le gustará más o menos efectivamente

algunos para incidir más en algunas de las propuestas

hay propuestas concretas y hay algo que ustedes no han hecho referencia

habla y desarrolla lo que debe ser un reglamento unos principios básicos del modelo de gobernanza de la transición energética algo que aquí no nos debe de gustar y a lo que no hacemos ninguna referencia porque es una de las partes

la parte de la gobernanza y es que esa parte es muy importante marca un orden

para que luego los parámetros nos coincidan para que no hagamos cada uno lo que nos da la gana y podamos tener datos lo más veraces posibles eso es lo importante y no han hecho ninguna referencia

qué dice qué dice ese reglamento que tengamos un relato propio que sea claro que sea didáctico

que la transición va a suponer a medio y largo plazo a los sectores cómo les va a afectar

las nuevas exigencias de capacitación y formación el impacto territorial y social que va a tener que sea participativo

este impacto va a tener en las estructuras económicas de la sociedad la estrategia para la descarbonización su elaboración su seguimiento debe estar abierta a los diferentes sectores económicos productivos y a la sociedad

que sea justa y equitativa que no deje a nadie en el camino solo tenemos que ver el sector de la automoción

pues en la cuneta en este momento en la cuneta hemos empezado por el final ahí está el sector de la automoción

eficiente de acuerdo con los compromisos que todos

a nivel internacional nos hemos comprometido en cuanto a energía y a cambio climático

objetivos cuantitativos a cumplir herramientas de desarrollo cuantificación de inversiones y plazos procedimientos rigurosos de seguimiento y evaluación de los resultados

el paquete de invierno de lo que llamamos la energía limpia para todos los europeos se fija en tres

da prioridad a la eficiencia energética lograr la implantación a gran escala de las renovables y brindar un trato justo a los consumidores

aquí en qué situación está oiga hemos aprobado una ley

energética eficiencia energética y derivado de esa ley hay

el gobierno para la implantación de las renovables no hemos hecho nada con los consumidores mire si yo voy a la ley que hemos aprobado en esta cámara

de alguna manera afecta a dos de las partes importantes de la transición energética y de los reglamentos y qué hemos hecho

ahí hemos hecho hemos legislado y además hemos puesto compromisos para estos sectores además les vamos a sancionar si no cumplen la ley

ahora hace menos de un mes que hemos aprobado esto vienen ustedes y dicen que vamos a hacer una comisión de expertos para que analice cómo va a hacer la transición energética propia vasca la vasca

esa transición energética en el país vasco se les ha olvidado como le decía el poner esa

que hemos elaborado todo un capítulo de sanciones porque no cumplan entonces qué hemos hecho hemos puesto

hemos hecho la ley no hemos hablado con nadie no hemos evaluado nada no hemos aplicado nada el reglamento de gobernanza nada lo hemos hecho a dedo

se trae aquí y se vota y punto pelota y ahora vamos a traer la comisión de expertos para qué para que nos corrija la ley para que nos haga el reglamento de la ley

es que ustedes en la iniciativa dicen vamos a hacer esta comisión de expertos

para que siendo conscientes de que la transición energética supondrá un gran cambio y que es la propuesta del pacto vasco de la energía deberá incluir entre otros análisis sobre la movilidad

si lo hemos legislado y hemos hecho el reglamento sancionador entonces qué vamos a hacer con lo que nos digan los expertos corregir la ley desarrollar los reglamentos oiga no tiene coherencia

mire yo creo que por otra parte tenemos que tener dieciocho comisiones de expertos la comisión de expertos al gobierno de españa

por cada comunidad autónoma

qué papel van a jugar los biocombustibles en la transición energética es distinto aquí que en la rioja

es distinto la pobreza energética en la transición energética

y va a ser en el país vasco que en navarra que en la rioja la implantación

señor otero yo creo que francamente nosotros desde luego

señor becerra criticaba la comisión de expertos del gobierno de madrid

el gobierno ahora está utilizando los datos de esta comisión de expertos el lunes hubo un debate en el foro elcano

fue de esta comisión de expertos en el que ha basado el plan

no está en un cajón no está en un cajón esta comisión de expertos ni las propuestas que dicen ni los análisis que hace no está en un cajón está siendo utilizado por el gobierno no lo informan así claro cómo lo van a decir pero es que los datos que dieron

en el foro elcano hablando de la transición energética y resulta que todos los datos están aquí

le gustará más determinados nombres o menos pero la realidad es la que es por lo tanto yo les decía qué pasa con las obligaciones que nos hemos comprometido en la ley de sostenibilidad energética qué va a pasar con esto por otra parte dice bueno el pacto vasco de la energía propondrá además un objetivo final de llegar

por otra parte nosotros consideramos y bueno en su proposición

se organizará un congreso sobre la transición energética vasca para la presentación del documento realizado

solo les ha faltado firmar solo les ha puesto que era raro

le ha faltado poner y que ya el lehendakari haga un aurresku y un irrintzi

es que francamente solo les ha faltado poner eso yo señorías de verdad

un reto importante pero que esto queda muy raro una comisión de expertos después de haber aprobado una ley una ley que afecta a casi el ochenta por ciento de lo que dice el reglamento de la unión europea para la transición energética los reglamentos por lo tanto creo que no debemos de perder el tiempo a mí me parece que esta propuesta el gobierno lo ha firmado encantado encantado porque es que nos deja anestesiados a la oposición para todo lo que queda de legislatura le ha puesto un caramelo golosísimo están encantados anestesiados

viene el problema que se ha generado por la automoción y nos proponen una ponencia oiga una ponencia

pues en eso estamos y esto es igual esto es igual cómo entretenernos a la oposición y ellos pues haciendo lo que se les ocurra creo señor otero que la voluntad seguro que no es mala me parece que es buena que se lo cree

porque no van a decir nada diferente de lo que se dice aquí diferente por lo tanto me parece que es perder el tiempo y que nuestra labor debería ser ser exigentes con que hagan una planificación de la gobernanza qué quieren hacer
hasta dónde quieren llegar amaitu mesedez y eso a estos señores

gracias presidente y buenos días bueno señor otero soy un poco más optimista que quienes me han precedido en el uso de la palabra

el contenido y el acuerdo alcanzado en un tema tan importante como el futuro energético de euskadi creo que la propuesta de un pacto de país por la energía

como decía la señora lópez de ocariz pues no sé si se hubiera debatido antes o después la ley

comparto con usted que es un día importante y que desde luego es un punto de partida para lo que debiera ser el futuro de la política energética en euskadi

mucho debate y además que lo ha suscitado normalmente con su grupo parlamentario pero que sin embargo en esta ocasión entiendo que se quieren superar los postulados partidistas para marcar entre todos la hoja de ruta de la política energética vasca yo creo que nos hemos cansado de repetir que era una asignatura pendiente los datos de la dependencia económica que todos repetimos en esta tribuna

es ya una obligación para las administraciones y para la sociedad en su conjunto

estuvimos a punto de aprobar la primera ley de cambio climático en españa y que por la voluntad de unos o la dejadez de otros quedó en un cajón cuando solo quedó

es fundamental comprender que está en juego uno de los vectores cruciales de modernización y progreso económico a nivel mundial y la ventana de la oportunidad entendemos que está abierta

que en eso estamos todos de acuerdo la política energética y las decisiones que se tomen trascienden a la comunidad autónoma vasca

entendemos que no debemos obviar las decisiones del gobierno de españa que tienen competencias en casi todo

desde europa el actual modelo energético comparto que es insostenible sobre todo si pensamos en el cambio climático en las consecuencias que estamos viviendo ya y los graves impactos que también tiene para la salud humana la importancia que la unión europea otorga al cambio climático se debe a la consideración de que es uno de los problemas

un problema del que todos hablamos hoy y que muchos han negado durante demasiado tiempo la mayoría de la sociedad considera que un sistema energético basado en el carbón en el petróleo y en las centrales nucleares pertenecen ya al pasado la política energética necesita una formulación a largo plazo y el desarrollo de una política de país de ahí la necesidad que un pacto de país históricamente siempre han existido desencuentros

con esta iniciativa con este pacto de país como eje principal exigimos una altura de miras la búsqueda de equilibrio y la toma de decisiones y apuestas concretas

ya que representan el setenta y cuatro por ciento de la energía primaria las energías renovables suponen solo un catorce por ciento y la nuclear el doce restante en consecuencia la descarbonización del sistema energético en ese horizonte temporal que nos decía la señora lópez de ocariz

supone un desafío para la economía y para la sociedad española y por supuesto para la vasca en treinta años se habrá de llevar a cabo una transformación cualitativa de la manera en que ahorramos generamos y consumimos energía con incidencia directa en el modelo de negocio tradicional del sector eléctrico en la movilidad de las personas y el transporte de mercancías en la climatización de los hogares en el tipo de energía que mueve a la industria en el uso de la energía en el comercio y los servicios la transformación ha de ser

el compromiso de todos los partidos políticos no está en duda la descarbonización del sistema energético se ha de llevar a cabo

en un escenario como el nuestro con unos datos de dependencia energética que todos conocemos con la obligatoriedad de tomar medidas relativas a las renovables con un tejido empresarial que es verdad que en euskadi

reconoceremos también que en este parlamento costó por lo menos veinte iniciativas que se reconociera la pobreza energética como una nueva cara de la pobreza

hoy en día la pobreza energética está dimensionada en los proyectos de presupuestos y se ha intentado hacer de la mejor manera posible aunque tenemos que reconocer que efectivamente la partida presupuestaria que se le da no asume el poder solventar

en el informe anual de dos mil diecisiete realizado por el propio gobierno vasco reconoce el aumento de consumo de la energía debido a la recuperación general de consumos la industria representa el cincuenta y seis del consumo eléctrico el sector servicios el veintidós por ciento y el doméstico

la iniciativa que hoy nos propone eh bildu va en consecuencia con la recomendación que planteó el ararteko a través de un informe extraordinario titulado la transición energética del país vasco hacia un modelo sostenible que es de octubre del año dos mil dieciocho el capítulo cuarto titulado elementos clave para el futuro energético de la comunidad autónoma vasca

el ararteko de forma textual recomienda un pacto social sobre la transición energética este pacto deberá contribuir a continuar el camino ya iniciado para la transición energética en euskadi y acelerar las medidas sobre las que existen más consensos

entendemos que a este pacto social habría que añadir la parte política hoy comparto con el señor otero daremos el primer paso para trabajar en ese futuro de euskadi

a la economía de euskadi y a la vida de los ciudadanos a los socialistas vascos nos parece también interesante algo que se recoge en la enmienda transaccional la revisión de la estrategia energética dos mil treinta

con los tiempos necesita ser renovada es importante actualizar los datos los objetivos y probablemente medidas para continuar avanzando en este asunto

de sostenibilidad energética y en cartera del gobierno vasco está la ley vasca de cambio climático

por tanto entendemos que es imprescindible tratar el tema de la energía buscando acuerdos y marcándonos metas

olvidándonos de utilizar la energía como arma arrojadiza y olvidándonos del momento electoral o no en el que

entiendo que para eso podría servir el pacto es fundamental pasar de los discursos a la toma de decisiones hemos hablado demasiado y demasiado tiempo sobre muchas cosas pero creo que hay que reconocer que ha faltado la toma de muchas decisiones es el momento de la apuesta real por las energías renovables comparto muchas cosas de las que ha dicho el señor becerra

de la mano del medio ambiente implicando a la sociedad a las administraciones y al tejido empresarial nuestro voto por supuesto será favorable a la proposición no de ley

en la confianza de que a partir de ahora trabajaremos de forma responsable por marcar la hoja de ruta del futuro de la política energética vasca nada más muchas gracias

bejon deigula hace apenas un mes aprobábamos la ley

como han hecho en tantas ocasiones tanto el lehendakari como la consejera como los portavoces de los grupos que apoyamos al gobierno para reivindicar un acuerdo de país en todas aquellas materias precisamente

en aquel debate la ley era ya una pata fundamental de ese acuerdo de país

debíamos hincarle el diente o nos hacíamos eco de la necesidad de que para el resto de cuestiones para el resto de patas que tienen que ver

diesemos pasos adelante y creo que en eso estamos hoy estamos dando un paso fundamental para la transición hacia un nuevo modelo energético que como país debemos encarar sin demoras hace dos años que venimos hablando de la necesidad de construir un pacto en torno a la energía y estoy convencido de que hoy ponemos la primera piedra

porque la lucha contra el cambio climático como ya se ha dicho aquí es una de las principales motivación para actuar en el área de la sostenibilidad energética no solo de la sostenibilidad sino de la producción de la distribución

esta transición requerirá actuaciones que permitan cambiar patrones y modos de consumo desplacen el uso de combustibles fósiles e integren de una manera

este cambio puede y debe producirse mientras se mantiene un cauce razonable de energía para los usuarios y se garantiza en todo momento la seguridad del suministro

creo también que es importante que este camino parta de este parlamento

y creo que es muy importante que en todo aquello en lo que hemos encomendado a una comisión de expertos que nos marque la hoja de ruta nos hagamos

a un lado para dejarles trabajar y si somos capaces de apuntalar un acuerdo interinstitucional y social la ejecución de los acuerdos en la buena dirección estará garantizada

si venimos desde luego como ha venido hoy el señor becerra ya de antemano de saque las cosas obviamente se nos pondrán más complicadas yo hoy venía a hablar del acuerdo de consenso

hoy le ha tocado los precios otras veces es efectivamente la revolución

que tanto en una cosa como en la otra tanto en la producción como en el precio

hay un elemento que tiene una importancia tremenda voy a hacer una adivinanza empieza por car y termina con bón con bón con tilde en la o y eso

nosotros nos estamos dispuestos a dar pasos hacia atrás en cualquier caso

en manos del lehendakari que además no está ahí porque sí esta ahí porque tiene detrás el apoyo de dos grupos parlamentarios que a su vez han tenido un apoyo

y la consejera tapia yo creo que lo hace voy a decir razonablemente bien dentro de diez años como les decía la última vez ya verán como hay quien dice que lo hacía mucho mejor incluso de lo que lo hacía

tampoco le pondría al señor otero de consejero de energía pero mire le diré

ha sido capaz desde la lealtad de negociar este texto que hoy sometemos a votación con los grupos que apoyan al gobierno con lealtad con confianza y hemos sido capaces de sacar adelante

y la voluntad de este gobierno como lo es la de los grupos que los sustentan y que a usted le crea tantas dudas es la que se plasma en este documento este documento

y hay encontrará donde hemos sido capaces de encontrarnos con quien ha manifestado desde el minuto cero y sigue manifestando que es importante que para tirar adelante en este tema

entre todos que creo que es para generar confianza mucho más importante que firmar y luego venir aquí

esa desconfianza normalmente señor becerra es la que acaba dinamitando todo este tipo de acuerdo y de verdad que lo siento yo

en el apoyo que el resto de grupos hemos dado al texto y en la confianza que hemos tenido mientras lo negociábamos besterik ez eskerrik asko

señora lópez de ocariz le concedo tres le concedo tres cuestiones uno la expresión el texto y sus partes no es una expresión no es una expresión muy afortunada

en euskera y tal vez debiéramos a ver hablado de los anexos a los que se refiere otra parte de la propuesta esa se la concedo hay otras dos que le concedo una sí nosotros estábamos hablando de pacto vasco de la energía

estamos pensando en nuestro territorio tenemos una perspectiva territorial diferenciada es evidente pero que también creo que independientemente de otros motivos también responde a unos criterios que son técnicos porque tienen bastante poco que ver la realidad energética del estado español en general

tienen bastante poco que ver la realidad de las emisiones del estado español que la nuestra que por cierto tanto en energías renovables como en emisiones los números del estado español son bastante mejores que los

pero evidentemente nuestra densidad de población nuestro tejido industrial

nuestra planificación y nuestra distribución territorial es muy diferente con lo cual las soluciones también tienen que ser

de la ocupación territorial que puede tener el despliegue las renovables por ejemplo por eso también renovable que promovimos en la ley le concedo también que hay un peligro que también compartía usted con el señor becerra

es verdad que el tema en cierta medida yo creo que no va a ser completo pero en cierta medida sí que

es una jugada política de riesgo vamos a decirlo así pero en cualquier caso yo vuelvo al principio al origen de la propuesta todas las alarmas están sonando entidades de prestigio nos están diciendo que o hacemos un esfuerzo compartido de país

a lo mundial que implique poner toda la carne en el asador es decir en lugar de aportar

que es verdad corremos algunos peligros que alguien después o algunos después

crean que se llevan el gato al agua para seguir haciendo las políticas de siempre yo creo que no

pacta yo entiendo hoy políticamente y es que tenemos un objetivo el objetivo es

el metabolismo económico vasco tiene que ser neutro en carbono eso

implica per se unas transformaciones muy importantes entonces yo creo que eso ya nos pone en la buena dirección pero es verdad que después puede haber tendencias

es que me diga usted que no hemos hecho ninguna referencia al reglamento de gobernanza recién aprobado por la unión europea

porque es verdad que en el primer texto original no se puso pero después

ya que tomamos en cuenta su enmienda lo incorporamos en el texto y lo puede ver y se lo leo

dos mil treinta para que se adecúe a los objetivos que ha explicitado la unión europea a través de las directivas dos mil dieciocho dos mil uno dos mil dieciocho dos mil dos y el reglamento dos mil dieciocho mil novecientos noventa y nueve

es el reglamento de gobernanza de la unión de la energía que es

pero no solo tiene esta referencia sino cuando se manda hacer la redacción del pacto vasco de la energía en uno de los puntos se recoge precisamente que en la meta volante de dos mil treinta todos estos objetivos sean tomados en cuenta con lo cual

usted me está diciendo y con respecto a un par de cuestiones con respecto a lo que ha dicho usted señor becerra yo estoy de acuerdo que esto tiene algunos peligros y que se siga haciendo las cosas como siempre y usted ha puesto

y lo ha puesto como ejemplo de que siempre se está mirando al mismo sitio a mí en el proyecto ekian no es eso lo que más me preocupa es verdad que en comparación el modelo alemán de propiedad de las instalaciones de energía renovable pues es un lugar donde mirarse en ese aspecto no en todos pero en ese aspecto sí pero

y de la manera que se ha hecho se puede hacer el problema es que la otra pata está sin desarrollar y la legislación para eso tampoco la tenemos toda en nuestra mano pero es verdad

a mí me preocupa más saber o reconocer que para veinticuatro megavatios que se han instalado haya que poner sesenta y siete mil placas solares y comer cincuenta y cinco hectáreas de terreno productivo

y a dos mil cincuenta pensamos que eso no debe de existir estamos hablando

a buscar la generación distribuida a utilización de pabellones tejados etcétera no solo la gran renovable concentrada en un lugar de producción sino efectivamente la generación distribuida

cómo adaptamos la red para darle la vuelta a eso entonces

la inspiración del pacto sobre cuya paternidad maternidad no tengo ningún problema en que sea compartido evidentemente porque todos veíamos la necesidad

un poco en el modelo danés o en la propuesta danesa que en el año dos mil doce

parlamentario firmó un documento y a partir de ahí las políticas han tenido cierta coherencia no exentas de problemas insisto

no todo está solucionado besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

el modelo de desarrollo de las energías renovables solo el de las energías renovables

no es un deseo es una realidad tenemos confianza pero la confianza no es inocencia la misma lealtad que ha mostrado el señor otero mostró nuestro grupo cuando pactó la ley de sostenibilidad energética exactamente la misma

confianza no es inocencia nosotros reconocemos los mismos peligros que puede reconocer el señor otero y que no piense el señor otero que además le felicitamos por esta iniciativa y

reconocemos la importancia de este tema y por eso firmamos también pero de ahí a salir de aquí dándonos palmaditas en la espalda pensando que ya está todo hecho hay

porque efectivamente yo también oí al lehendakari hablar del pacto por la energía

no me preocupó oír al lehendakari hablar de esta pacto me alegró oírlo pero sí me preocupo oírlo

porque si dejamos la transición energética en manos exclusivamente de las empresas tenemos un problema es demasiado importante la transición energética como para dejarlo en manos

pero no tienen un interés público ni tienen por qué tenerlo y cuando buscamos que nadie se quede atrás no podemos pretender que sean las empresas las que hagan ese trabajo

coincido con la señora rojo efectivamente se han hecho trabajos para solventar la pobreza energética el problema que tenemos es que a día de hoy

del tipo de modelo energético que tenemos es el modelo el que es injusto es el modelo el que crea la pobreza energética por eso esta es una oportunidad perfecta

para cambiar el modelo y evitar la pobreza energética no tener que paliarla no me ha entendido bien la señora lópez de ocariz respecto al comité de expertos español

en cuanto a propuestas reales no ha servido para nada el gobierno entrante igual que el gobierno saliente no utilizaron las propuestas utilizan los datos técnicos

evidentemente aunque solo nos sirva el pacto este vasco que aprobamos hoy para conseguir unos buenos datos técnicos y científicos a nivel de euskadi

eso no es la transición energética usted ha hablado de gobernanza

fíjese a este comité de expertos de personas expertas le hemos puesto las siguientes encomiendas que hagan las estimaciones económicas de lo que supone la transición energética que establezcan los instrumentos para la financiación que concreten las competencias que necesitamos los cambios legales y los cambios fiscales

aquí vamos a tener a las diputaciones encima y por encima de la lth no está ni el cambio climático

al comité de expertos para que nos digan los cambios fiscales vamos a tener que tratarlos aquí y ahí si no hay liderazgo político no hay nada que hacer y entonces yo señor otero miraré hacia allí y diré qué hacemos con las propuestas de modificación fiscal qué hay que hacer en este país

nadie ni la onu entonces hoy nuestro apoyo es necesariamente crítico necesariamente crítico

con la inocencia lo vuelvo a decir muchas gracias eskerrik asko becerra jauna euskal talde

extraer a esta circunstancia alemania cambió el articulado del autoconsumo en el reglamento lo ha cambiado lo ha cambiado a propuesta de alemania y da vía libre a lo que llamamos impuesto del sol

ahora habrá ese impuesto al sol a partir de

se acuerdan de eso el modelo alemán todo lo que nos decían lo que han dicho y en esta tribuna también oiga a petición de alemania

señor grajales los expertos tendrán en cuenta la sociedad al sector oiga todo lo que ustedes no tuvieron en cuenta ni consideraron oportuno en la ley de sostenibilidad energética no tuvieron en cuenta ni algunos grupos de la oposición fíjese todo eso ahora van a tener los expertos en cuenta bien y además dice no

las actividades de saneamiento la gestión de residuos y descontaminación la construcción sabe lo que no aparece el sector agrícola sabe por qué

por eso mismo no aparece el sector agrícola ahora ya me van a decir

como van a hacer mover un tractor de doscientos cincuenta caballos con electricidad que me lo cuente

porque sabe que pasa que estamos basando todo esto en unas energías

incertidumbre que no sabemos cómo van a responder y lo estamos fiando todo a un futuro que es hoy incierto mañana no sé pero hoy es incierto y por lo tanto me dan igual señor becerra los expertos de madrid hay muchísimas cuestiones que son comunes muchísimas

en cada territorio pero hay un ámbito muy importante

que es común es así el comportamiento del biocombustible pues va a ser aquí

y otras tantas y la pobreza energética afecta igual a los vascos que a los riojanos igual igual más aquí

es cara aquí es caro aquí nos cuesta todo el doble que en otros sitios porque nuestro nivel es tan elevado

y de ahí que insistamos tanto desde algunos grupos en bajar los impuestos porque estamos ahogando a una parte muy importante de la sociedad y eso les hace

pasando pobreza energética porque no tienen disponibilidad económica porque les estamos abrasando a impuestos y porque los podemos bajar porque estamos recaudando más

aliviaría la pobreza energética no ponerle una placa solar que también pero ya me dirá usted que si le bajamos el impuesto va a tener liquidez y va a poder poner la calefacción en vez a diecinueve a veinte

eso va a poder hacer por lo tanto no todo lo fiemos a no sé qué energía que va a venir y que va a ser

aquí nada es barato aquí todo es muy caro porque tenemos que alimentar muy pocos mucha administración pública es así

de administración pública tenemos que tener tejido económico porque si no morimos nos ahogamos es así es bastante básico por lo tanto yo lo que quiero decirles es que el reglamento ahora

señor otero el reglamento o sea qué pasa que la ley de eficiencia energética no necesitaba de todo esa aportación de la sociedad porque no dejará nadie en el camino pero esto también hay que hacerlo de abajo arriba y la ley de sostenibilidad energética que afecta a la construcción que afecta

tiene mucha reglamentación pendiente va a afectar de manera muy importante

el sector de comercio usted cree qué el sector de comercio sabe que hay una ley

usted sabe que el propietario de una vivienda sabe que hay una ley de sostenibilidad energética

auditorías que si no lo hace va a ser sancionado

por no hacer un certificado de eficiencia energética sabe que va a pasar pues que nos echarán todos la mano a la cabeza cuando llegue el momento

ustedes no esto se ha hecho no con el reglamento básico que establece

no se ha hecho y esta ley de sostenibilidad energética afecta parte muy importante de la sociedad por no decir

sí gracias otra vez presidenta bueno señor becerra usted nos hablaba de confianza o de versus inocencia

nadie ha pedido ni un ejercicio de confianza ni una demostración de inocencia

lo que pide es determinación y trabajo en aras al futuro de este país porque

cada vez en manos gente por lo tanto aquí venimos a hacer política

pero lo que no puede ser es que ante algo que todo el mundo dice o siempre hemos venido diciendo que era fundamental un pacto en esta ocasión por la política energética que supere

que los saquemos de la bronca política para que estemos trabajando donde hay que trabajar para poder construir lo que nos viene después solo se queden tanto usted como la señora lópez de ocariz en lo negativo es que

que su voto iba a ser favorables pues sinceramente no le entiendo porque aparte de criticarlo todo

no entiendo muy bien por qué va a votar a favor que me alegro pero creo que su discurso no es acorde con ese voto que parece que decía luego nos hablaba de lo que se va a poder

hasta donde yo sé ustedes tienen representación en las juntas generales de los tres territorios trabajen propongan y convenzan que es creo lo que tenemos que hacer todos los partidos políticos en las instituciones hablaba de poner hablar en manos de la ciudadanía que hay que trabajar en esto cuando nos hablaba de alemania hablaba de que efectivamente queda un largo trecho que a partir de aquí no está nada resuelto yo creo

los tres portavoces hemos coincidido en que es un punto de partida

pero efectivamente queda mucho por hacer por tanto creo que no damos por hecho ni por concluido nada porque efectivamente es un tema que además en euskadi ha sido muy controvertido que ojala

este pacto de país hace muchos años igual hubiéremos podido avanzar en temas como las energías renovables

y puntos de no acuerdo en lo que tiene que ver con la energía y luego

unas semanas esa ley inicialmente planteaba que solo afectará a la administración pública y creo que se dijo que una cosa positiva es que el ámbito de aplicación afectará a más porque no solo la administración pública tiene que tomar medidas en lo que tiene que ver con la energía con la sostenibilidad

es que euskadi es una comunidad autónoma con un tejido empresarial probablemente no comparable a otras comunidades autónomas yo creo que no se puede decir

porque creo que este gobierno tiene un apoyo fundamental al tejido empresarial y claro que va a afectar a los ciudadanos

es que efectivamente yo creo que la conciencia social que existe en la calle debiera aplicarse también dentro de las administraciones por tanto creo que este pacto de país me parece positivo

hay que confiar en eso sí señor becerra en los expertos por eso se elige a personas expertas en esta materia veremos cómo trabajan y esperemos a esos primeros seis meses que nos traigan o que nos expliquen qué es lo que están haciendo y confiemos en que en un año este trabajo haya concluido porque esto

en este caso del vasco o del gobierno de españa sino que creo que formará parte del futuro de este país las alarmas ya no son alarmas ya es que

de eso hay que hablar comparto con usted y debiéramos de ponernos a trabajar y como digo espero que dejemos a un lado las políticas partidistas y que tengamos altura de miras para lo que tiene que ser hablar de energía y como le digo ojala su voto sea favorable pero efectivamente su discurso no tiene nada que ver con lo que parece que van a votar

inocencia nombre femenino condición de lo que está libre de culpa o pecado

no es usted inocente pero no se preocupe nosotros tampoco lo somos

cada uno arrastra su cruz en cualquier caso cuando yo le hablaba de lealtad del señor otero a negociar esta iniciativa de hoy en ningún caso ponía en duda

ni pongo la que tuvimos hace quince días cuando hablábamos de la proposición no de ley que nos presentó el partido popular por ejemplo sobre el plan territorial sectorial

ponemos una primera piedra sin palmaditas como decía usted sin pausa y sin prisa porque yo creo que a veces o yo tengo la sensación por lo menos una sensación muy personal de que

modelo que conocemos actual a un modelo futuro que todavía ninguno sabemos cómo va a ser podemos tener una idea unos una otros otra pero tenemos que definir dos cosas una

cuál va a ser ese modelo que todavía más va a depender de muchas cosas probablemente

desarrollando poco a poco esto es camino intermedio y si me permite que le ponga el símil histórico

pese a todas las alarmas que están encendidas entre ruptura y reforma

es decir esta sociedad tiene que seguir viviendo esta sociedad tiene que seguir trabajando y la electricidad

la alternativa son las velas como decía alguien el otro día y no creo que ninguno estemos dispuestos en este momento entonces yo creo que esto hay que tomárselo con cierta calma porque usted corre corre y

a gasolina quemada vamos a ver no sabemos

sacamos de la confrontación política un tema que puede ser en un momento determinado puramente técnico

con técnicos que van a designar ustedes con técnicos que vamos a designar nosotros con técnicos que a parte de sus conocimientos tienen sus planteamientos ante la vida sus ideologías y sus formas de ser de hacer y de trabajar y ahí está el quid de la cuestión

o igual no lo son igual nos marcan diferentes alternativas diferentes caminos diferentes estados de la técnica eso es lo que no sabemos

que queremos desbrozar y me imagino que a todos nos pasará que efectivamente si el pacto se da si llegan a un acuerdo pues habrá cuestiones

las energías renovables ha sido nula en los últimos años y es verdad

pero en el momento que el lehendakari junto a veintitantas empresas presenta una única actuación

del país en su conjunto en este momento ahora resulta que eso ya no vale no vale porque hay veintidós empresas por detrás ustedes de todos modos de las veintidós se le ha olvidado a usted nombrar a alguna ha nombrado tres o cuatro únicamente

alguna cosa en fin creo que es importante también que vayamos trabajando el ámbito de la colaboración público privada para este tipo de cosas y que tengamos claro o que digamos desde el principio como en su caso no oiga yo no quiero grandes

cada uno cuatro planchitas en casa y fuera pero bueno en cualquier caso yo insisto creo que hay que

sin inocencia con confianza y si no quiere palmaditas señor becerra tranquilo yo le ofrezco

porque creo que efectivamente que si todos ponemos de nuestro lado estamos en la buena dirección para que realmente en este país se dé

en la que si todos compartimos como digo todos partidos instituciones y el ámbito social

y más o menos lleva la brújula en la dirección a ese punto de llegada que no conocemos del todo pues creo que seremos capaces de llegar no me queda más tiempo pero termino señora presidenta señora lópez de ocariz

me entenderá el señor sémper cuando le digo que lo suyo no es política es el pp
muchas gracias eskerrik asko grajales jauna

señorías señores consejeros señora presidenta presentamos esta proposición no de ley desde el grupo popular en primer lugar para reconocer para reconocer e impulsar la caza como una actividad económica social y medioambiental

al desarrollo sostenible y al mantenimiento del entorno rural la caza es la primera actividad de la humanidad como sustento del hombre

hacia la civilización isiltasuna mesedez la caza está reconocida como una actividad económica
que además de generar renta y empleo contribuye al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales y es un instrumento imprescindible para la gestión del territorio

genera trescientos millónes de euros al año el sector de la caza agrupa a más

en el país vasco de estos entre un sesenta sesenta y cinco por ciento se moviliza cada año para practicar esta actividad

un cuarenta y tres por ciento lo hace en el país vasco exclusivamente

autónomas si nos fijamos por territorios gipuzkoa aglutina el mayor porcentaje de aficionados que practica la caza un cuarenta y cinco coma uno por ciento dieciséis mil quinientos sesenta y tres cazadores bizkaia un treinta y cuatro por ciento doce mil cuatrocientos noventa y seis y álava un veintiocho coma nueve por ciento siete mil seiscientos veintiséis cazadores

además de poseer la obligada licencia están federados en muchos casos hay trescientos ochenta asociaciones y clubes deportivos gipuzkoa encabeza el ranking con doce mil seiscientos treinta y siete federados

y álava dos mil cincuenta y cuatro les decía que la caza tiene especial incidencia en el ámbito rural

y hay un amplio número de municipios donde este colectivo supera el diez por ciento de toda su población en términos generales en este estudio

por debajo de la media española que es el dos coma tres por ciento y muy por debajo de países como noruega donde la población cazadora representa el cuatro coma ocho por ciento o dinamarca que representa la población cazadora el tres coma uno por ciento

que representa un tres coma dos por ciento les decía que de los trescientos millónes que decíamos que genera la actividad cinegética vasca cada año doscientos cincuenta se quedan en euskadi y cincuenta millónes se emplean en ir a otras comunidades autónomas tres coma siete millónes van a hacer su actividad al extranjero y en cuanto al empleo genera mil ochocientos cuarenta y dos empleos de ellos mil cuatrocientos diez dentro del país vasco

es importante el papel que el sector cinegético puede desarrollar a la hora de aplicar medidas de control de la fauna silvestre para prevenir episodios de riesgo sanitario

a informar y sensibilizar a todos los agentes en contacto con la fauna silvestre y en especial los cazadores por ser los agentes de proximidad que mejor pueden valorar con las autoridades y con los servicios

para detectar cualquier síntoma que pueda poner en alerta ante un episodio de riesgo

sin embargo a pesar de la importancia del reconocimiento del sector cinegético existen voces que tratan de estigmatizar este sector

las diversas contribuciones que nos aporta además de poner en riesgo el empleo de miles de familias por eso desde el grupo popular queremos poner en valor la actividad cinegética tan importante para el mantenimiento para el respeto y la conservación del medio natural además

y la riqueza que nos aporta desde nuestro grupo hicimos una una propuesta a los grupos del gobierno y también de la oposición presentaron enmiendas a nuestra iniciativa y hemos llegado a una enmienda de transacción en la que décimos que consideramos desde el parlamento vasco que

con la normativa con la regulación y bajo con las consideraciones técnicas y científicas

que desarrollen en el medio natural porque efectivamente la caza contribuye al mantenimiento del medio natural de una manera importante también

que entendemos que la sobreabundancia de determinadas especies animales en el medio natural debe ser gestionada desde criterios técnicos y científicos con el fin de evitar

al ecosistema dentro de las medidas de gestión basadas en dichos criterios la caza puede ser considerada como una herramienta más para la consecución de una adecuada gestión del medio también instamos al gobierno vasco y a las diputaciones forales

formados por responsables de diversos departamentos del gobierno vasco expertos y científicos con el fin de analizar la problemática de la peste porcina así como una gestión correcta y multidisciplinar de la misma es verdad que

ante casos que se han detectado en bruselas y en algún otro país de la unión europea ha puesto alerta a todos los países de la unión europea para que extrememos la atención

y estemos atentos desde todas las administraciones de los demás estados miembros para que ante cualquier atisbo o cualquier duda pues nos pongamos en contacto con los servicios veterinarios y los servicios administrativos en este caso

y se avise para poder evitar cualquier

del sector porcino especialmente nosotros creemos que bueno que es por una parte un apoyo al sector de la caza

y también por la contribución que pueden hacer en este caso a gestionar el medio natural y concretamente en este momento a estar vigilantes ante posibles conatos de algunas enfermedades que pueden aparecer en nuestro territorio

podemos hablar mucho más de la caza y de las aportaciones que nos hace insistir en muchos más números pero creo que hoy lo importante es que hemos llegado a un acuerdo y que

un respaldo para el sector de la caza en el país vasco

egun on berriz ere debatimos en este segundo punto una propuesta del grupo popular para el reconocimiento institucional de la caza nuestro grupo considera que en euskadi este reconocimiento institucional este impulso no es en absoluto necesario no es en absoluto necesario porque si algo tiene la caza en euskadi es que está

y que además en general es falsamente ensalzada incluso con datos que no se ajustan a la realidad porque la propuesta del grupo popular se basa en una serie de datos

que como digo son cuanto menos ampliamente cuestionables porque si nos vamos al impacto real socioeconómico que tiene la caza en euskadi

el propio sector y la señora lópez de ocariz lo ha dicho evalúa en sesenta mil el número de practicantes falso solo hay diecisiete mil licencias federativas un tercio de las que dice para que nos hagamos una idea el golf en euskadi tiene más

y no se me ocurre a mí que un grupo en este caso pongamos el nuestro

una proposición no de ley que dijera el parlamento reconoce el valor estratégico del golf y de quienes lo practican

y esto es lo que tiene esta proposición que es extemporánea e innecesaria

en euskadi solo en euskadi la real federación española de caza en dos mil cuatro evaluó que en toda españa

tenemos en euskadi un diez por ciento del empleo de la caza de toda españa habiendo comunidades cinegéticas

estos datos no se ajustan para nada a la realidad habla también de la actividad económica que genera la caza trescientos millónes de euros euskadi tiene ciento treinta y cinco cotos castilla y león

y genera seiscientos millónes de euros es un coto alavés veinte veces más rentable que un coto burgalés

en absoluto en absoluto los datos de la caza en euskadi están completamente inflados y este sector aquí

en otros sitios pero lo que más me molesta es que se hable de la caza como un agente de desarrollo rural de desarrollo rural y que se hable por ejemplo de que hay municipios vascos que tienen más de un diez por ciento de población cazadora

la señora lópez de ocariz no lo ha dicho pudiera ser pudiera parecer que es barakaldo que es eibar o que es irún bien es amoroto ciento veinte habitantes en bizkaia solo hay un municipio con más de un diez por ciento amoroto con ciento veinte habitantes en álava hay tres el más importante es kuartango doscientos dieciocho habitantes y en gipuzkoa hay veinte el más importante es gaintza con cuatrocientos diecinueve habitantes esa es la importancia real

y a mí me gustaría comparar y en mi enmienda lo he hecho así la importancia que tiene la caza con la importancia que tienen otros sectores de población que disfrutan de ese espacio público que es nuestro mundo rural nuestros montes nuestros ecosistemas nuestros bosques la importancia que tienen los senderistas los montañeros montañeras los ciclistas

más de una vez al sector de la caza el sector de montaña el número de federados y federadas de montaña en euskadi duplica al de la caza

para el disfrute del paisaje de la cultura del ecosistema y las costumbres sin tener que molestar a nadie y eso

y eso no lo puede decir la caza por lo tanto la riqueza que podemos que podemos conseguir en este país protegiendo el medio ambiente

a día de hoy con una actividad como la caza que tiene más pasado que futuro más pasado que futuro porque si uno lee el primer párrafo

y la conservación del patrimonio natural forestal e histórico

y decir que dios después de siete días de haber creado todo lo que existe en el mundo en el séptimo día en vez de descansar cogió la escopeta y se lio a tiros con todo lo que había creado

y no es así si queremos proteger y conservar las especies basta con que las dejemos tranquilas y si hay sobrepoblación se puede hacer frente a esa sobre población de muchas formas distintas

tenemos que ver a día de hoy qué es lo que nos dicen los expertos los agentes forestales que día a día están en los cotos de caza las trampas los venenos los lazos que encuentran en este parlamento se ha hablado de delitos medio ambientales y han comparecido los agentes forestales y han venido a decir cuántos delitos provocados

en las diputaciones vascas porque no se tramitan los expedientes de delito medioambiental que se deberían de tratar y cuántas especies protegidas son abatidas

lo realmente sorprendente de esta iniciativa y con esto termino cuando nos ponemos a hablar de prevenir episodios de riesgo sanitario relacionado con jabalíes potencialmente transmisores de la peste porcina africana

y viene derivada de que los cotos de caza están introduciendo jabalíes centroeuropeos

son mucho más grandes que los jabalíes ibéricos y les gusta matar animales más grandes y la peste porcina africana la han traído a españa los jabalíes importados de centroeuropa por el sector cinegético y que ahora se nos diga en esta proposición

es cuanto menos sorprendente por lo tanto nuestra postura la postura del grupo elkarrekin podemos es que no es necesario en euskadi ni ensalzar ni reconocer la caza y que a la transacción que han llegado los diferentes grupos nos vamos a abstener ahora bien sí reconocemos que en esa transacción hay una serie de cosas buenas fundamentalmente

que ni euskadi ni este parlamento reconoce el valor estratégico del sector de la caza y de quienes lo practican que este parlamento no pone en valor la importante aportación que la caza realiza en la sociedad vasca y que este parlamento no

con esto nos damos por satisfechas gracias eskerrik asko becerra jauna

se han permitido esperas nocturnas se ha permitido cazar

afección a cultivos y demás eta ikusten ari garena da

en origen hablaba de dos situaciones de dos cosas

ejercicio de la caza y la otra cuidar proteger la fauna

en todos sus aspectos también en los sanitarios yo creo

iniciativa merece la pena recordar que en el país vasco hay una ley de caza que

que prácticamente lo aborda todo y de hecho aborda estos dos aspectos que se planteaban en la iniciativa la ley de caza habla del arraigo social de la caza habla de la conservación de la fauna y habla del estado sanitario de las especies que es parte o casi lo fundamental de lo que aquí hoy se traía

ha sido reforzada en muchas ocasiones por los reglamentos por los decretos

y también con una edición muy específica muy especial que es una guía de caza donde se plantea además desde una perspectiva ética y medioambiental cómo

incorporar hacer convivir a la caza en el espacio natural

exentos ausentes con deficiencias en la regulación de la caza pero bueno puede ser recurrente de vez en cuando darle una vuelta filosófica a estos aspectos aunque no vaya mucho más allá de lo que ya está reglamentado y de hecho

una enmienda transaccional con cuatro grupos en los que

los elementos y consideraciones que ya están en la ley de caza y que es que la caza es absolutamente compatible con el medio ambiente que incluso forma parte de esa conservación del medio ambiente y que además es compatible

otras actividades que se producen en el medio natural por lo tanto está bien que reiteremos eso que ya estaba establecido

es evidente que tenemos que atender a cualquier contingencia que pueda haber en relación con el estado sanitario

obvio que hay que hacerlo a su vez como hay competencias

a nivel de los territorios forales hay ordenanzas forales

parece absolutamente razonable que haya una coordinación entre las diputaciones y el gobierno

formas de encuentro en los que se traten de los problemas

en un momento determinado y en este ese problema sanitario del que se ha hablado en fin

tan de cajón de madera de pino que me parece bien que ocupemos el tiempo en hablar de esto una vez más pero lo que no creo es que vaya a salir nada novedoso porque todo lo que se puede decir

muchos años y me parece que hoy en este

en este punto vamos a cazar muy poco eskerrik asko prieto jauna

viajar menos y no correr detrás de las bestias a partir de ahí evolucionó generando nuevos modelos económicos

creo o fue creando un mercado de vivienda que ha terminado en lo que conocemos como normas subsidiarias

sus excedentes de producción los iba vendiendo a sus vecinos

inventando la venta de proximidad y ha terminado inventando los transgénicos

se empezó a aburrir de vivir siempre en el mismo sitio y paulatinamente decidió viajar inventó el turismo y ha terminado inventando los cruceros

surgieron inconvenientes por ejemplo como ya no cazaba

lo que le obligó a volver a cazar para defender su economía y su vida que no necesariamente para alimentarse esta es en resumidas cuentas la evolución humana

dejar de cazar para alimentarse hacerse sedentario y volver a cazar para poder alimentarse tras miles de años de evolución humana y a pesar de todo lo que ha cambiado todo la caza sigue formando parte de nuestra sociedad aunque no como una actividad para lograr alimento aunque la caza se coma y nutra grandes platos de grandes restaurantes

la caza es hoy básicamente una afición un ocio que al dedicarse a eliminar

siempre ha sido controvertida porque claro la sociedad humana compuesta de miles de millónes de almas cada una tiene una visión de sus cosas y normalmente tiene otra visión

eta industriak eta horiek guztiak komunikatzeko azpiegiturak y es que al dejar de ser cazador

porque claro en ese universo ocupado por actividades económicas y humanas

lógicamente interfiere en la actividad económica y social humana

arrasa los cultivos o provoca sustos a seres humanos que observan atónitos a corzos paseando por la avenida de gasteiz o a un jabalí cruzándose la carretera mientras uno bajaba tranquilamente en coche

esta compleja convivencia hay que organizarla y de nuevo la organiza desde el antropocentrismo en el que estamos asentados

quien determina el modelo de convivencia de todas y todos para que en la medida de lo posible

en un mundo pequeño lleno de espacios y seres vivos con intereses todos ellos muy diferentes el antropocentrismo surge básicamente porque si dentro de la misma especie homo sapiens las visiones y los intereses son tan diferentes como lo vemos aquí mismo qué no será si hay una discusión entre un homo sapiens y por poner un ejemplo un corzo o un jabalí o un lobo

y la más capacitada solo de momento señor becerra solo de momento

la ordenación del tráfico de la biodiversidad debería hacerse partiendo

y dejar que cada especie se expanda en la medida que su biología

y es que aunque hay teorías para todos los gustos la más predominante y la de más sentido común viene a decir que ciertas actividades económicas y sociales del hombre son incompatibles con una naturaleza dejada a sí mismo

en la medida que parte de su expansión depende de la ocupación de sistemas económicos humanos

por todo ello homo sapiens ha ido a lo largo de la historia tomando decisiones sobre la eliminación de excedentes de fauna silvestre

se centraba especialmente en los animales directamente dañinos al ser humano el oso

pasando por otorgar autorizaciones de caza a las clases poderosas hasta avanzar ya a mediados del siglo pasado de veda que intentaban discriminar especies y épocas del año

introduciendo por cierto nuevas variables de interferencia como fue

y al mismo tiempo se democratizó y socializó mucho la práctica de la caza al tiempo se fue generando un sector económico alrededor de la práctica cinegética tanto de armas alquiler de terrenos y ahora ya como todo lo cool también en la moda la moda también forma parte de la economía de la caza

a nuevas misiones entre las que debe destacar que las administraciones responsables de las vedas deben de tener los mejores datos técnicos para tomar sus decisiones y

y como en todo sistema de organización social les corresponde aprenderse

es si se permite la caza cuestión que aunque se debata mucho creo que es obvia y en general si no en totalidad los técnicos de la materia se decantan porque así sea en general independientemente del negocio de las empresas de los puestos de trabajo que a su alrededor se generan que también

en este parlamento pero estoy soslayándolo en las decisiones iniciales que hay que tomar nuestra posición por tanto es indudable la caza es necesaria para organizar el tráfico de seres vivos que campan por la naturaleza tranquilamente y libremente para gestionar su abundancia sin poner el riesgo ni su supervivencia como población ni la biodiversidad

la ética de mejorar el medio ambiente cuando alguna especie animal daña la ética del medio ambiente no está reñida con la práctica cinegética

porque también hay una ética del sostenimiento de la economía rural y de la

incluso al querer proteger espacios para incrementar su biodiversidad resulta que nos encontramos que al tiempo se crean refugios para todo tipo de fauna

por otra que incrementa demasiado su población y tenemos que acudir a silenciosos arqueros profesionales para que eliminen los jabalíes como en salburua y todo ello dirigido por técnicos de los que nadie duda de su ética ambiental y es que la propuesta que inicialmente se traía aquí

o no y nosotros entendemos que era un pelín tramposo

los cazadores y las cazadoras los que están siendo atacados es la caza a la que se le imputa al elevar el rango del debate como actividad exenta de ética

para que la actividad de la caza continúe por eso nuestra enmienda y la que hemos transaccionado habla de la caza como actividad que es la que debe ser debatida sin caza

mientras que sin aficionados a la caza la actividad cinegética no tendría por qué finiquitarse

requiere de normas que posibiliten esa coexistencia en esa organización los cazadores y ahí se aprovecha el ocio y la afición

para lograr esa convivencia y si no hubiera esa afición a la caza habría que inventarla o contar con profesionales como en salburua la caza ordenada desde normas que dictan quienes previamente han estudiado la situación de las poblaciones afectadas

rural para ejecutar esas normas y lograr la compatibilidad se requiere de quienes apliquen las mismas que nos son otros que los imprescindibles cazadores

por aclarar un término señor otero no sé qué

decir con que la iniciativa la presento en un momento

en junio de dos mil diecisiete a una iniciativa que presentó el grupo elkarrekin podemos

dice lo siguiente el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que en colaboración con los agentes sociales del sector de la caza establezca mecanismos para poner en valor la importante

el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que en colaboración con los agentes sociales del sector de la caza divulgue y transmita mediante campañas informativas los valores de la caza sus características tradicionales y respetuosos con el medio natural e impulse la práctica

generaciones no es de ahora cuando he tenido oportunidad me he posicionado y me voy a posicionar siempre en esa línea no tengo otra es la que tengo

mi entorno es cazador reconozco los valores que aporta la caza y los voy a mantener siempre estemos en

señor becerra usted pone en duda todos los datos claro si no los hace usted

usted no reconoce que la industria armera forma parte del sector de la caza

el sector de la pólvora forma parte del sector de la caza que somos casi los únicos

y que es un potencial importantísimo y eso no lo reconoce como no reconoce eso pues pero estamos ahí y claro habla de visitantes del campo no los cazadores son

los depredadores de la naturaleza oiga no no

dejemos tranquilos a los animalitos en el campo y que libremente por el campo pues mire yo ahora fíjese me sonrió cuando veo al corzo que viene se come el corazoncito de la escarola las yemas de los pimientos

nos saludamos nos miramos ya forma parte de la familia casi lo voy a empadronar el jabalí también pasa por allí

y había campos de trigo y de cereal pues no nos hacía ninguna gracia como tampoco le hace gracia a mi vecino que le comen y le destrocen los maíces sabe

y eso hay que ordenarlo lo llame como lo llame pero hay que ordenarlo

yo le invito tengo el horario casi a la hora que puede ir para entablar una relación

delitos del sector cinegético o sea no estigmaticemos al sector de la caza porque mire señor becerra

porque una senadora suya ha cometido no sé qué delito

a todos los cazadores y no es así yo creo que ya vale

en su justo término ya vale eh y señor otero

realizarla en los criterios técnicos establecidos con las normas vigentes

lo insistimos pero es obvio yo no me voy a y luego hay una pregunta por qué estigmatizamos a la caza y no estigmatizamos a la pesca

no son animalitos vivos qué pasa cuál es la diferencia por qué

no molesta la caza molestan mucho los cazadores y luego señor

vienen y van con una tranquilidad pasmosa cruzan la carretera con una tranquilidad impresionante al lado de mi casa tienen el paso y me dice la gente ya has visto a los jabalíes que cruzan por delante de tu casa pues ahí están

estos no eskerrik asko

bien lo que les decía nos ponemos a reinterpretar y acabamos en el génesis

que la naturaleza está dejada de sí misma dejada de sí misma

y nos ha venido a decir que los animales salvajes viven exclusivamente para comerse a los domésticos y a los seres humanos

campa a sus anchas y claro quién va a venir a poner orden hombre el ser humano

de almas que cada año hacen desaparece a cientos de especies

alguien tiene que poner orden en el tráfico de seres vivos esto se ha dicho literalmente alguien tiene que poner orden en el tráfico de seres vivos y tiene que ser el ser humano por supuesto no va a ser la naturaleza mire

hizo un estudio la diputación de álava de en qué días

los guardas forestales haciendo un análisis de por qué eran los lunes vinieron a determinar que eran las batidas de cazadores de los sábados y los domingos

los lunes por los sitios donde habitualmente no solían cruzar les atropellaban los vehículos fíjense por dónde

vaya hay que poner orden en esto verdad hay que poner orden en esto

viene de un campo de posguerra donde sí intentaban cazar pero no les dejaban

porque los conejos eran para los señoritos que venían de la ciudad a cazarlos los fines de semana y hoy en día la caza sigue siendo una actividad de gente de ciudad que va al campo a cazar

mayoritariamente y dónde gastan el dinero en la ciudad en comprar el material de caza en la ciudad la ciudad y en el alojamiento y lo que tenemos que ver hoy en día es hacía el futuro y no hacia el pasado porque yo he dicho que la caza tiene más pasado que futuro y si empezamos a hablar de evolución dice el señor tellería que el origen de la caza fue el avance hacía la civilización la civilización llegó justo cuando los cazadores decidieron hacerse sedentarios entonces surgieron las ciudades y con las ciudades llegó la civilización la civilización llegó cuando el ser humano aparcó la caza de una vez

eso es lo que estamos debatiendo y no la tiene no la tiene porque a día de hoy si miramos al siglo veintiuno si miramos al futuro proteger el medio ambiente observar la naturaleza es mucho más gratificante pero además es económicamente mucho más rentables para el mundo rural

no acabaremos de dar el paso de la evolución evidentemente esto no tiene nada que ver con cuestiones éticas y las he dejado deliberadamente aparte porque las cuestiones éticas le corresponderán a cada uno pero miren cuando una actividad

en esa misma necesidad está reconociendo que se está convirtiendo la misma actividad en un museo viviente en una reliquia y ustedes

todo el derecho del mundo de presentar una proposición no de ley sobre la caza

da lo mismo la evolución va por otro lado si no lo entendemos

pagaremos esas consecuencias gracias eskerrik asko becerra jauna

bai oso laburrean quería intervenir sobre todo aclarar una cosa y

felicitar a la señora lópez de ocariz porque la verdad es que nos hace pasar unos ratos impagables las anécdotas de su granja

dos para decir que todo lo que yo he dicho acerca de la caza que usted dice que no hemos hablado de la pesca me parece perfectamente aplicable a la pesca igualmente quiero decir que no es cuestión de una actividad concreto u otra no es cuestión de estigmatizar nada usted ha venido a hablar de la caza yo he dicho lo que nuestro grupo entiendo cuáles son

o más que la caza ciertos comportamientos de ciertos cazadores que eso es aplicable a la pesca

problemas de furtivismo problema de introducción de especies alóctonas etcétera

con el tema de la posible o los posibles problemas que pueden estar generando la caza con respecto a la sobreabundancia de jabalíes

todos sabemos que la hembra de más edad es la que se reproduce con los jabalíes entonces si después de batidas o después de esperas o después de lo que sea se abate esa pieza hay una tendencia a que todas las hembras de la manada que tienen más de un año

entonces eso parece que puede estar generando un efecto contraproducente es decir que la caza en algunos lugares al someter a estrés a las manadas que evidentemente a pesar de que alrededor de su casa o de su pueblo se paseen con tranquilidad

pues al final puede estar provocando eso sin más nosotros desde luego pontificar con este tema y como hemos dicho lo dejamos en manos de las mesas técnicas

egun on berriro voy a intentar ser breve y calmado porque me ha dicho mi psicóloga que cada vez que me enfrento al profesor becerra

me ha pedido que haga esfuerzos de autocontención primero le voy a citar las fake news de hoy cada día tiene fake news

no diecisiete mil diecisiete mil son las de pesca no confunda caza y pesca

datos oficiales del departamento muy bien siguiente hay muchos delitos de caza porque

lo llevaron a la fiscalía y sobreseyeron el caso

vale pues eso se llevó a la fiscalía un agente forestal

un trocito de verdad contada tercera traen jabalines

para traer la peste porcina africana eso me recuerda a en los años ochenta cuando

entre ellos estaría usted les echaban víboras en el campo aposta para jorobarlos

autóctono también la trajeron los pescadores o cómo es esto vale

porque habrían ido a pescar a otro sitio pero no la traían aposta a ver si

vamos a ir quitando a ver mi psicóloga me ha dicho que esté calmado voy a estar calmado vale y luego me habla de que he dicho que la naturaleza dejada a sí misma que hay que poner orden claro que lo he dicho usted ha leído alguna vez en su vida algún libro de ecología siquiera un resumen una cita de margalef una pequeña cita pues descubrirá que eso que he dicho

yo soy un copiador pero copiador de gente lista mire la naturaleza funciona

y unos seres vivos se controlan a otros y eso genera controles de población y el ser humano es una especie más

con muchos sistemas escopetas poniendo vallas y también con leyes y órdenes de veda ese es su sistema de ordenar el tráfico

en un mundo natural donde el homo sapiens manda más

impone más cosas porque tiene más armamento a su favor contra los demás y que a sus anchas y se comen a las ovejas

porque así es el sistema y los leones comen ratones y el ratón no puede hacer una orden de veda para

a los suyos a cazar leones no lo puede hacer y nosotros sí esa es una diferencia sutil pero es una diferencia entonces es pura ecología lo que hacemos

léase el libro ecología o entre la biodiversidad

y descubrirá muchas cosas y sabrá interpretar usted que es un gran profesor

un gran profesor sabrá interpretar lo que yo aquí hoy he dicho y además he dicho una cosa que a lo mejor no la ha entendido he dicho el hombre

y cuanto más sapiens era seguramente era menos sabio y dejó de cazar eso es lo que he dicho eskerrik asko

nos hace pasar unos buenos ratos pero es verdad que el tema que ahora traemos aquí a colación es bastante más serio y pasamos de un tema anterior que es el de la caza de jabalíes y animales a una caza fortuita e inusitada

y una caza fortuita como decía

el eslabón más importante del ecosistema cultural que es la cultura de base

consecuencias graves para el eslabón más básico del ecosistema cultural el más necesario la base del mismo no sería posible

que garantice un circuito de continuidad que comienza con los espacios de pequeño formato en vez de medidas como este decreto lo que se necesitan son estrategias compartidas

su relevancia garanticen su desarrollo incentivando y dando cabida al sector a cientos de músicos y artistas que cada año salen de espacios de creación de escuelas de música locales y de las escuelas superiores de diseño de teatro musicales etcétera

y medidas normativas que terminen con la inseguridad jurídica sí y a la vez con la precariedad que comparten las salas los bares y los locales de pequeño aforo

sociocultural de esa escena recursos y medidas que acaben con la precariedad de los y las artistas

la precariedad del sector y más concretamente esa parte del sector al que me estoy refiriendo si atendemos a una serie de gráficos recogidos en el estudio al que me he referido

la actividad económica principal el cincuenta por ciento de los mismos corresponde a actividades de creación artísticas y de espectáculos junto con

muy por debajo están otro tipo de actividades del sector del ámbito cultural como las artes gráficas

incluso de edición de libros y publicaciones si atendemos a la temporalidad de los contratos

un ámbito de tiempo entre dos mil trece y dos mil diecisiete llama notablemente la atención que el sesenta y ocho por ciento de dichos contratos tengan la duración de un día o menos y entre dos y siete días otro dieciséis por ciento es decir el ochenta por ciento de los nuevos

tienen una duración de menos de una semana y además atienden a un extracto social que es el de la juventud ya que el cincuenta y cinco por ciento de los nuevos contratos

defendiendo algo complicado de defender desde un punto de vista cultural y es que ayer

dijo en entrevista radiofónica que la propuesta de que solo fueran doce conciertos al año fue de eudel y que por lo tanto es eudel quien debería optar por eliminar esa cantidad o proponer otra o incluso no proponer ninguna

en cuanto a la cuantía de actuaciones que se pudiesen dar en este tipo de locales o como segunda opción incluso usted daba una segunda opción que era que eudel

un criterio de flexibilidad para su aplicación y dejara en manos de cada ayuntamiento la regulación de esos espacios concretos a los mismos a las entidades locales beraz

hoy nos toca debatir en torno a una iniciativa que presenta eh bildu sobre el reglamento y desarrollo de la ley de espectáculos y actividades recreativas

y recortar las actividades culturales en bares y locales de pequeño formato un decreto que a todas luces

a los diferentes municipios barrios y ciudades en euskadi

y de los agentes culturales como artistas creativas y aficionadas a la cultura que vamos a sufrir un recorte sin precedentes puesto que se van a limitar a doce actos al año lo que supone una actuación al mes por local de conciertos exposiciones sesiones de dj bertsolaris coros actuaciones musicalizadas monólogos improvisaciones teatrales

y otras muchas expresiones artísticas una medida que nos hace perder a todas la cultura es el conjunto de prácticas

que nos vincula a una manera de entender la sociedad y el mundo un conjunto

que nos permiten reconocernos y compartir con los demás un modo de vivir y de pensar a través de la cultura se expresan toman conciencia de sí mismas se reconocen como un proyecto inacabado se ponen en cuestión buscan nuevas significaciones y crean obras que las trascienden por lo tanto la cultura así entendida tiene una importante dimensión política de construcción de comunidad y convivencia muchas veces invisible pero que es imprescindible tener en cuenta empujar un cambio social y desde las instituciones nos toca defenderla facilitar y garantizar su acceso a toda la ciudadanía

y apenas transcurridas unas semanas desde que se tuvo conocimiento de la nueva normativa son numerosas las personas creadoras impulsoras y consumidoras de cultura las que se oponen a esta limitación las mismas que se han organizado

desde la plataforma arteak ireki que hoy nos acompaña este decreto parte de una profunda incapacidad

aquella que crean producen y distribuyen personas y agentes en la escala local es el elemento clave y estratégico a cuidar en una política cultural

lo que ocurre es que la política cultural del gobierno vasco solo entiende de criterios mercantiles de grandes eventos a los que sacar rendimiento político y deja de lado

a quienes necesitan de apoyo y acompañamiento como es el caso de la economía del pequeño comercio el turismo la vida en los barrios las fiestas de nuestros pueblos la cultura nuestra cultura que van a ser alcanzadas directamente por este sinsentido si no hacemos algo por evitarlo pero a elkarrekin podemos nos gustaría ir más allá y al margen de lo concreto de que se elimine la prohibición

es la reflexión sobre el modelo cultural y en relación con él el modelo urbanístico y el papel de la cultura en la misma en definitiva el modelo de ciudad y de sociedad a la que aspiramos desde elkarrekin podemos creemos que es necesario modelo cultural que defienda el derecho a la cultura como uno de nuestros derechos fundamentales un derecho básico que se concreta principalmente en el derecho de un acceso del acceso universal a la cultura de toda la ciudadanía con un papel de implicación activa ya sea como públicos o como creadores culturales un acceso entendido como la posibilidad de formación creación

superando todo tipo de barreras tanto reales como simbólicas y de manera distribuida por todo el territorio una cultura entendida como un servicio público donde se diversifica la oferta en toda una red de centros culturales bibliotecas y espacios independientes de todo tipo así como en el espacio como lugar principal para el desarrollo de la cultura viva comunitaria revirtiendo la tendencia de la cultura como producto mercantilizado y espectacularizado para el consumo el ocio y el turismo del gran museo y el macroevento

por ello tenemos que poner en valor los circuitos culturales de escala local protegerlos y fomentarlos como imprescindibles en cualquier municipio de euskadi como se ha demostrado a lo largo de la historia no se puede vivir de los macroeventos y la cultura

en la historia de la cultura en euskadi son decenas los ejemplos que podríamos poner para ilustrar el cómo muchos grupos musicales teatrales y artistas en general comenzaron su andadura en bares locales alternativos recordemos los gaztetxes y en espacios populares en general qué hubiera sido de todas ellas

simplemente no habrían tenido ninguna oportunidad que es lo que ustedes quieren hacer ahora privar a nuestras creadoras de la oportunidad de hacer cultura no solo no les garantizan sitio en los grandes fastos culturales sino que ahora

que han conquistado por derecho yo misma invertí

aprendiendo y disfrutando en los pequeños circuitos culturales en gasteiz acudiendo a los martes culturales del parral a conciertos y obras de teatro a las sesiones de poesía recitada o musicada en el estitxu a las noches de improvisación y monólogos en el molly malone

tenemos que luchar y construir alternativas y espacios contra los que nos quieren idiotas

la cultura es siempre una herramienta de disidencia

una manera de compartir de entender otras realidades y de ser libres

por ello hemos firmado una enmienda de transacción donde a la eliminación de la prohibición y el decreto añadimos dos puntos que nos parecen a nosotras a elkarrekin podemos importantes uno de ellos habla

de recintos y locales en un plazo de seis meses adaptando el reglamento de desarrollo de ley de espectáculos y actividades recreativas junto con todos

y aficionadas a la cultura así como y esto nos parecía también importante la adaptación y actualización

a la perspectiva de género con el fin de promover medidas que impulsen

por las mujeres creadoras desde elkarrekin podemos queremos proponer otro modelo cultural para euskadi que ponga la cultura en el centro de la vida un modelo menos paternalista y mercantilizado y más feminista y ciudadano un modelo

del sustrato de eso que somos para proyectarnos en aquello que nos gustaría ser un modelo que cultive prácticas culturales en todos los ámbitos desde lo profesional

y la experimentación desarrollar el pensamiento crítico y promover una experiencia emancipatoria

presidenta señorías compartimos conceptos

la concepción de la cultura como un elemento vertebrador de la civilización como un elemento vertebrador del progreso las artes del espectáculo además

de creatividad y es una creatividad que luego tiene

íntima directa con la economía con el ocio con las celebraciones con las costumbres el arraigo

cuando hablamos de la cultura y cuando hablamos de las manifestaciones de la propia cultura como las artes del espectáculo

como la poesía obviamente estamos hablando de un patrimonio universal e irrenunciable

que todos apreciamos valoramos protegemos cuidamos

podemos estar abordando en este pleno quiero

quiero recordar que en honor a la verdad y para que cada uno asuma

que se aprobó por decreto que todavía no ha entrado en vigor que tiene un periodo todavía amplio para poder ser revisado y que

de espectáculos es un reglamento que ha sido compartido con los ayuntamientos que están bajo la organización

y que ha sido tratado entre el día y la noche aprobado rápidamente y generando estas expectativas que ahora está generando sino que es un reglamento que obviamente como todos tenía una filosofía un pensamiento no solamente abordaba el número de espectáculos a celebrar sino otras muchas cuestiones de importancia fundamental

algunas de las responsabilidades que tiene el gobierno a la hora de servir a los ciudadanos administrando la política como es la seguridad los aforos la insonorización la convivencia

todos esto elementos es decir que estamos hablando de un reglamento que

el número de espectáculos sobre esto hubo un tiempo importante para que los ayuntamientos se pronunciaran yo creo que fue mucha gente la que tuvo opción a ver y valorar esto

y bueno pues finalmente por las razones

no se puso en cuestión el número de espectáculos y esto es lo que finalmente apareció en el reglamento con posterioridad sí se ha puesto

fundamentalmente desde quienes son protagonistas en las artes del espectáculo se ha puesto en cuestión

en el que ya participan más agentes de la propia sociedad

la política una de las utilidades de la política es gestionar la misma y gestionarla no solamente bajo el criterio

así hemos sido elegidos sino también del conjunto de la sociedad en la medida que les afecta y que también tienen que tener participación en esas políticas

el procedimiento de cómo se ha generado esta discusión sino lo que importa es si tenemos márgenes si tenemos posibilidades y si tenemos voluntad de

viendo probablemente más intereses y más perfiles sobre el aspecto y tratando de buscar un entendimiento amplio un consenso amplio una participación amplia

en esa voluntad por supuesto está el grupo parlamentario socialista es razonable que se revise es razonable porque

hay muchas experiencias aquí se ha citado alguna de otros lugares y por tanto digamos que no es un elemento de principios

ninguno no es una cuestión de principios es una cuestión de armonía entre los distintos agentes de la sociedad

con todos los factores que influyen sobre un espectáculo y que son varios además del de

artistas bueno nosotros estamos por la labor de esa revisión incluso nos hubiera gustado haberlo hecho de una forma más unitaria porque no estamos yo creo que tan divergentes en el fondo que estamos más en la forma

de valorar los plazos entre otras cosas porque como he dicho antes todavía falta mes y pico para que se ponga en marcha este reglamento y ahí había

hemos hablado de la posibilidad de hacer la reflexión sobre la revisión o sobre

algunas consideraciones de carácter semántico más que

porque en el fondo yo creo que hay una voluntad que aquí ha sido reconocida también en alguna intervención parlamentaria del propio consejero de cultura de unas manifestaciones recientes y desde luego de la consejera de interior también

el mismo interés la misma responsabilidad de abordar

haciendo participar de nuevo a los ayuntamientos que tienen mucho que decir y que yo diría me atrevería a decir que lo van a tener que decir y en público porque aquí hay un trabajo de campo en el que se habla en privado pero luego a la hora de la verdad surge controversias algunos que en privado manifiestan problemas dificultades

y tendrán que hacerlo de forma público cuál es su interpretación de la conciliación de todos los intereses que están en torno a los espectáculos y a lo que conllevan los espectáculos entonces

se dé que se haga ese emplazamiento al gobierno a revisar

que se haga a los ayuntamientos y también que participen los agentes sociales que intervienen en esta actividad y que no son solamente los agentes creadores sino que también son los agentes económicos en los que a través de sus establecimientos ponen la parte escénica para poder hacer esos espectáculos por lo tanto creo que hay un consenso amplio sobre el fondo del asunto eso nos lleva a nosotros por lo que he dicho de no habernos podido poner de acuerdo

de la enmienda transaccional a fijar una posición de abstención que es una posición de abstención hacia lo redactado en algún aspecto pero no hacia el fondo del asunto que es que hay que revisar

y hay que aprovechar la ocasión para buscar el mayor consenso y el mayor acomodo de todos los que trabajan viven
funcionan alrededor de los espectáculos muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

con ese objetivo es cuando se promulga la ley diez barra dos mil quince el pasado veintitrés de diciembre de dos mil quince de espectáculos públicos y actividades recreativas de euskadi una ley que entre sus preceptos recordarán que trataba de lograr un equilibrio entre ese principio

compaginar de la mejor de las maneras y entre otros de los aspectos que se tocaban

estaban los de mejorar la coordinación entre los diferentes niveles institucionales sobre todo teniendo en cuenta que los ayuntamientos son seguramente para la ciudadanía la institución de primera mano a la hora de realizar organizar o acoger este tipo de eventos en cualquiera de los casos en la propia

se necesitaría de un desarrollo reglamentario que es el que hoy nos viene a colación aprobado el cinco de febrero de dos mil diecinueve ese primer reglamento vasco de espectáculos públicos

horretan sartu izan ziren la participación es uno de los temas que ha salido encima de la mesa en torno a la aprobación de este decreto quién ha participado

algún tipo de participación y aquí creo que tenemos que dejar claro que aunque el decreto fue aprobado en febrero de dos mil diecinueve

cuando se abre ese trámite de consulta pública para la elaboración del propio decreto y posteriormente aproximadamente medio año después se saca a exposición pública ese primer texto del decreto es en este punto donde cualquier persona puede hacer aportaciones cualquier

alegaciones alegaciones que por cierto serían además contestadas individualmente como exige el procedimiento en estos casos

una reflexión en torno a los diferentes puntos que se recogen en el reglamento y a posteriori por qué no traerían una modificación en el texto

en cualquiera de los casos creemos que el reglamento aprobado por el consejo de gobierno el pasado febrero

porque desde ciertos sectores se ha tachado a este reglamento de ultra regulador creo que era la expresión que se utilizaba mientras que

son todos los aspectos que regula fundamentales en el desarrollo y la acogida de espectáculos públicos y actividades recreativas y todos ellos necesitaban de una

todo en aras de ofrecer una mayor seguridad jurídica en la aplicación de la propia ley diez barra dos mil quince no solo para las instituciones no solo para los ayuntamientos sino también para organizadores también para hosteleros cualquier persona que quiera organizar una actividad pública o una actividad recreativa en este sentido también ponía el acento este reglamento

también trataba de mejorar la coordinación con los ayuntamientos en aras a ser esa primera puerta de entrada para el ciudadano o ciudadana que quiera organizar un evento de este tipo y creemos que todos ellos son importantes y todos ellos fundamentales para

de este tipo de actividades por lo tanto esa caracterización de ultra regulador no podemos compartirla hala eta guztiz ere hauek guztiak

con eudel ese proceso de reflexión en torno

en aras a poner el foco en ese artículo ciento cinco que tantas interpretaciones ha suscitado

provocar una reflexión en torno al mismo que pueda dar respuesta a las mismas todo ello tratando de hacer conciliar los intereses de tres colectivos

los agentes empresariales los agentes sociales y los agentes institucionales los tres objeto de esta reglamentación y finalmente lograr un equilibrio como decía al comienzo de mi intervención en este caso entre la promoción de la cultura las artes y la música y por supuesto el derecho al descanso vecinal utzi dezagun beraz

buenos días a todos gracias por acudir a este debate

interés los argumentos que han esgrimido unos y otros tanto los partidos que

como la oposición y voy a intentar a través de esta intervención aportar quizás algún argumento no sé si diferente pero sí complementario al que han utilizado ustedes que se concretan más o menos si me permiten este resumen en que

que en este reglamento ha participado todo el mundo y que la señora consejera pasaba por ahí y su única responsabilidad ha sido aprobarlo y bueno

pues que conviene revisarlos y los partidos de la oposición en este caso eh bildu y

mucho más fácil de entender y mucho más fácil de responder recordarán ustedes una canción de eskorbuto

mucha policía poca diversión un error un error mucha policía poca diversión represión represión bueno pues a veces bueno me alegro que recuerden con

es la que se lleva la mala fama y el error y la represión entiéndase represión señora consejera por supuesto que soy del partido popular

represión con comillas pues es la que parte muchas veces de las leyes que se aprueban en cámaras como esta

como al que usted pertenece y al final la policía en este caso la ertzaintza o la policía municipal

a dar cumplimiento de un error represivo en este caso señora consejera

porque a algún político se le ocurrió la brillante idea de cometer este despropósito hay una vieja frase de corte liberal pero también con origen foral que viene a decir que las leyes las normas las mejores leyes y las normas

pocas breves y claras dicho de otra manera intentemos que los poderes públicos y en este caso los políticos los responsables de aprobar las leyes manoseemos lo menos posible la iniciativa ciudadana

y en este caso algo la libertad y la iniciativa ciudadana que debe fluir con absoluta normalidad y naturalidad

el ámbito cultural es verdad que las sociedades complejas las sociedades complejas suelen ser fundamentalmente las modernas

por moderna también tiene que ser capaz de articular las normas para permitir una convivencia normalizada

a algunos les gusta ir a pie otros les gusta ir en transporte público a otros les gusta ir en coche y los ayuntamientos

para hacer posible esa convivencia esa manera diferente de entender las ciudades

los gobiernos también en este caso leyes y reglamentos de desarrollo para permitir por ejemplo la normalidad y la normal y mejor convivencia entre quienes quieren el descanso

nocturno o a otras horas el problema no es en sí la regulación sino la mala regulación cuando un gobierno en este caso el gobierno vasco aprueba un decreto de desarrollo de una ley

y atenta fundamentalmente a dos aspectos la economía y la cultura

nuestro apoyo a la proposición no de ley de eh bildu y podemos nuestro apoyo sin matices porque oiga mire todo el mundo sabe lo lejos que estamos el partido popular

bildu y podemos y somete a consideración la ley de la gravedad pues tendré que aprobarlo pues bueno hoy lo que nos viene a someter podemos y bildu una especie de ley de la gravedad en forma de proposición no de ley oigan no tengo un matiz que hacer sino

de los conocidos pero como les decía en esa búsqueda del equilibrio conviene recordar algo que es fundamental cuando

con quien sea decide emprender un negocio y decide abrir un local en este caso un local

a qué retos se enfrenta pues tiene que comprar un local o tiene que alquilarlo tiene que

un reto que además está plagado plagado de incertidumbres pues porque

consume de otra manera porque la calle va dejando de ser un espacio y los locales

ofertas y hay otras ofertas y hay otras amenazas entre comillas para estos negocios

que comprendamos y entendamos la inmensa dificultad el reto casi heroico que supone hoy día abrir un negocio de hostelería una cafetería un bar

que para que ese negocio le vaya mejor y estoy hablando ahora exclusivamente de la parte económica decide aportar algo añadido un valor añadido a su negocio

aportar un valor añadido a su negocio para que la gente vaya lógicamente y consuma y además si ha de ser posible que se divierta y que vuelva y que sea un lugar de encuentro que sea un lugar que la gente puede socializar

puede pasárselo bien que no es ningún pecado y esto introducimos normas los ayuntamientos introducen normas

pero la pregunta es a quién le pareció

a usted le pareció una buena idea prohibir por ejemplo que cada jueves en un bar de vitoria de san sebastián o de bilbao o de cualquier pueblo de euskadi alguien no pueda por ejemplo

o alguien no sé a un cuentacuentos voy a hacer algo que le parezca más amable

estamos hablando de un decreto que prohíbe a un hostelero que pueda tener todos los jueves o todos los martes o todos los días

o un tipo o una tipa contando cuentos o haciendo monólogos y a alguien esto le parece una buena idea y por eso estamos aquí hoy no estamos aquí por otro motivo

que es tan o más importante que la económica tan o más importante que la que lleva a alguien hacer un esfuerzo

y emprender un proyecto empresarial que por cierto nutre las arcas municipales con los impuestos que pagan

porque van a poder seguir pagando impuestos porque van a dar vida a mi ciudad pero vamos a hablar de la cultura este intento vamos a ver dicho de otra manera

sobre todo de determinadas expresiones culturales y ahí están los ayuntamientos las diputaciones el propio gobierno vasco

yo no sé la niego señor consejero en este caso una voluntad de expandir de permitir un desarrollo normalizado y a ser posible muy fuerte

pero hay otras expresiones y hay otra manera de entenderlo también que se sale del circuito oficial que no necesita del circuito oficial

que necesita que los poderes públicos en lugar de poner permanentemente palos en las ruedas

y esto es de lo que estamos hablando de esa voluntad que algunos tienen en este caso ustedes señora consejera

para regularlo todo para que no fluya con normalidad y con naturalidad este tipo de expresiones y entonces ya no cabe más reflexión nosotros vamos apoyar la iniciativa de eh bildu y podemos no para que se abra un proceso de reflexión y vuelvan a sentarse no no para que esto se pare para que este despropósito desaparezca lo borren

pero que esto no se materialice yo creo que es tan sencillo como eso no prohibamos que quien monta un negocio pueda darle

en su local y no prohibamos también o no controlemos

el desarrollo normalizado y natural de expresiones culturales como en este caso que parece que es la que más
les asusta la musical muchas gracias eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzar buru anderea berriro ere hoy ha pasado una cosa inaudita y es que el representante del partido popular se ha dado cuenta
que eh bildu también carece de sentido común o sea no precisamente todo lo contrario que tiene sentido común y que actúa con todo el sentido común

su jefe en madrid el señor casado porque entonces igual van a entrar en espasmos él mismo de todas maneras agradezco su apoyo señor sémper el tono del debate también y

a lo que supone este reglamento vía decreto

dentro de un mes y hay margen hay margen

y que quizás quitemos importancia a lo que ha generado

de alguna manera este revuelo llamémoslo así pero yo creo que sí que importa porque en el fondo de la cuestión también está

y una manera de entender la propia cultura en sí eso por un lado y el modo de entender la cultura que tiene este ejecutivo pero

y esto lo hago a modo de crítica a todos los partidos políticos coaliciones políticas y por lo tanto a modo de autocrítica

la cultura ocupa en nuestras agendas políticas porque en los discursos siempre hacemos unos discursos muy pomposos diciendo la importancia de la cultura como elemento cohesionador de la sociedad desde convivencia etcétera tal pero luego eso no se ve reflejado en los recursos

para revertir como comentaba en el primer turno de palabra

que se vive en el sector decía el representante del partido nacionalista vasco que

aquí hay un conflicto de intereses y que ellos abogaban por normativizar no sé si esto es una hipernormativización o no sé

nosotras consideramos que no se cumple ese principio de libertad y convivencia porque

las diferentes partes de alguna manera se sientan cómodas en la situación que

pretende regular por lo tanto como he dicho antes una de las partes aquí se ve afectada de manera muy negativa y por lo tanto consideramos que esto para nada ayuda en la convivencia porque volvemos a reiterar nosotros compartimos muchas de las cuestiones que en dicho reglamento se recogen muchísimas pero la recogida en el artículo ciento cinco punto dos no tiene ningún sentido si

generan problemas de convivencia entre la ciudadanía claro

porque es verdad que generan ruidos también de cara a los vecinos que viven en las viviendas superiores pero tendría sentido regular oye como esto genera hemos regulado todo esto pero vamos a decir que no que terrazas solo se pueden poner sesenta días al año o que

no no tiene sentido no tiene ningún sentido como decía el señor sémper

doce máximo dos al mes por qué si el resto de condiciones las cumplen y

a cabo este tipo de actividades culturales hoy aquí se va a aprobar un mandato muy claro a este gobierno

ese artículo ciento cinco punto dos del reglamento se va a aprobar ese mandato y posteriormente como hemos dicho se puede aprovechar la situación generada para

todavía más allá ya seguramente desde el departamento de cultura y desde un punto de vista cultural no de normativización desde el departamento de seguridad

kontu bat ez dok amahiru sorteó la dictadura sa y otros tantos

la censura retirad esta limitación que carece de cordura y no intenten poner puertas a la cultura abrir las puertas

señor sémper desde luego había visto bastantes cosas en este parlamento en el poco tiempo que llevo pero a un parlamentario del pp del ciento cincuenta y cinco

de la ley mordaza ser adalid de las libertades culturales de euskadi era de lo poco que me faltaba por ver me pregunto si usted ha dedicado un solo minuto a leerse el reglamento que hoy viene a debate

a repasar los tres puntos que va a aprobar hoy con su voto favorable el primero de ellos habla de dejar sin efecto la prohibición de doce conciertos o eventos

en los bares que no tienen licencia para realizarlos usted sabe que esto supone una modificación del reglamento y que además

en el que diferentes actores han tomado parte agentes sociales agentes culturales agentes empresariales

va a votar a favor insisto el de solicitar a eudel que se repase este decreto junto con artistas hosteleros le recuerdo

que desde dos mil diecisiete se iniciaron los trámites de consulta pública de exposición pública se ha trabajado con eudel

se ha trabajado con agentes empresariales se ha trabajado con el propio departamento de cultura

ha realizado diferentes reuniones de coordinación entre diferentes departamentos por lo tanto

ya estaría realizado y finalmente se me ha olvidado bajarlo me lo he dejado allí arriba el tercero de los puntos habla de la perspectiva de género en junio de dos mil dieciséis emitió ya un informe en el que analizaba lo que es la normativa desde la perspectiva de género por lo tanto un tercer punto que insisto con su voto a favor le recuerdo que ya está realizado en cualquiera de los casos nosotros también optaremos por la abstención

tenemos que matizar los puntos que hemos mencionado en nuestra primera intervención creemos que desde la responsabilidad este decreto debe ser revisado y creemos que ya está en marcha este proceso de revisión junto con eudel junto con los puntos de vista que tienen los diferentes ayuntamientos y en este punto

ayuntamientos de absolutamente todos los colores y habría que tener en cuenta también qué opinan todos ellos y cuál es el punto de vista de muchos de ellos señor sémper también creo que yo tampoco es que tenga demasiada experiencia pero a nivel municipal siempre es necesario una reglamentación como la que hoy viene a debate creemos que desde luego para tomar decisiones siempre va a ayudar tener una reglamentación de este tipo

en justa correspondencia al interés del portavoz del partido nacionalista vasco

no es una cuestión créame no creo que sea una cuestión de experiencia la experiencia como todos los aspectos de la vida ayuda también para la política es una cuestión de sentido común usted ha dedicado mucho tiempo a meter la pata déjeme que le diga que

la saca y esto se soluciona señora consejera yo quiero cerrar esta intervención haciéndole una petición

miren cambiemos cambien entiendan lo que está pasando aquí entiendan lo que pasa en la calle entiendan cuál es la reclamación

y en lugar de prohibir en lugar de coartar en lugar de limitar impulsen impulsemos la cultura de una manera diferente

pero permitan ustedes e impulsen por qué no expresiones culturales en la calle en los bares en las cafeterías allí donde haya alguien que tenga algo que decir y tenga una manera de expresarse que cuente al menos no con sus palos en las ruedas y al menos no con su veto creemos honestamente lo digo

en el que el politiqueo creo de verdad creo que no tiene cabida bueno yo entiendo que a ustedes no les gusta perder las votaciones pero a veces incluso al pnv también le puede pasar

foméntenlo que nos irá bien a todos y yo les invito me permito la oportunidad de invitarles a san sebastián

algún bar con música en directo y ya verán que los que allí vamos ni tenemos rabo cuernos ni tridente muchas gracias eskerrik asko

consejeros consejeras es un tema el que traemos a la última hora de la mañana un tema

se refiere a los problemas de los conflictos de interés que hay en la profesión entre médicos profesionales de enfermería entre personas que toman decisiones

es un tema que ya el gobierno vasco planteó

siendo el gobierno vasco pionero en el estado español con la aprobación del código ético el veintiocho de mayo del dos mil trece

un código ético con los siguientes objetivos para los altos cargos para los miembros del gobierno para el personal eventual y demás altos cargos entidades autónomas etcétera etcétera

transparencia y gobierno abierto honestidad y desinterés

respeto y ejemplaridad estos son los objetivos que en este momento el gobierno vasco aplica a sus cargos y a sus dirigentes desde dos mil trece

no me hubiese animado a plantear la necesidad que en el sector salud este asunto

cumplir se debe extender si no hubiese habido dos casos especialmente escandalosos en los últimos meses el primer caso

afamado oncólogo afamado especialista en cáncer

no informó que en los últimos años había recibido millónes de dólares de las farmacéuticas sobre los cuales había escrito artículos de investigación

proponía en sus investigaciones y el segundo asunto que me preocupó

hace dos semanas del guggenheim de nueva york lleno de pacientes

de pacientes de un opiáceo que había comercializado

unas de las financiadoras del guggenheim del louvre

de la universidad de cambridge de escuelas y de otras filantropías

que ha tenido un problema la reservada familia de multimillónarios sackler a la que se señala como beneficiaria

por la que se declaró emergencia en salud por trump recientemente el comercio del oxycontin es el que generó la más alta prescripción de opioides en estados unidos un analgésico para el dolor crónico con una operación de marketing entre mil novecientos noventa y cinco que se lanzó al mercado hasta el dos mil uno

en el dos mil doce los médicos de estados unidos prescribieron doscientos ochenta y dos millónes de recetas

a favor de este opiáceo fue escandaloso y llegaron a todos del país a sus institutos de investigación y hubo un artículo en mil novecientos ochenta que solamente dijo una cosa

los opiáceos no condicionan adicción

otras setecientos veces por otros investigadores no es cierto es mentira por ese artículo que se publicó en una revista científica se vendieron millónes y millónes de opiáceos generando muertes dependencias

impresionante solamente entre el dos mil trece y el dos mil quince varias empresas farmacéuticas pagaron cuarenta y seis millónes de dólares a más de sesenta y ocho mil médicos en propaganda

es un asunto de una envergadura importante jamás me hubiese atrevido a plantear este asunto

y se plantease el tema de la declaración de

en el mismo ochenta que es la primera vez que una revista científica

lo siguiente los médicos no deben tener ningún conflicto de interés económico y por lo tanto ninguna asociación pecuniaria

la reducción de las relaciones financieras de los médicos con las empresas es urgente unas relaciones más éticas con la industria farmacéutica con la industria de la tecnología médica

es urgente para asegurar la primacía de los intereses públicos

una que se hable más de este tema que se haga público este asunto

y dos que se haga un estudio cuidadoso de la situación y nosotros pues humildemente hemos planteado algunos criterios

los conflictos de interés que se presentan con mayor frecuencia en la actualidad y que provocan inquietud y notoriedad pública en aquellas relaciones con la

en todo el mundo también en euskadi en forma no siempre evidente la industria farmacéutica al buscar optimizar la venta de sus productos

de estos de manera tal que influye en la toma de decisiones del médico sesgando su juicio profesional y colocando en un segundo plano las necesidades del paciente se amenaza en forma imperceptible la necesaria libertad

con el fin primario de su profesión investigaciones que se han hecho de varios tipos y en varios países han llegado a las siguientes conclusiones recibir regalos de representantes farmacéuticos se asocia a una actitud condescendiente hacia los productos promovidos por aquellos cuántos amigos

con mi práctica médica que tengo yo criterios propios cuántos lo han dicho

se incrementa sustancialmente después de que los médicos visitados por estos representantes hayan aceptado muestras médicas gratuitas

y realizados por profesionales destacados tiene el mismo efecto por todo eso es importante y voy acabando

tengan conductas acordes con los valores que deben orientar a la práctica profesional no aceptar regalos de la industria farmacéutica ni de empresas fabricantes de equipos médicos

se sugiere limitar y organizar la recepción de visitadores en hospitales y consultas de centros de salud no solicitar financiamiento de la industria farmacéutica o de tecnología médica

etcétera etcétera la propuesta es una propuesta sencilla

una línea general ética tranquila que agradecemos especialmente a todos los grupos parlamentarios el consenso al que hemos llegado

las cuestiones que planteamos en la enmienda es que se aplique el código ético del gobierno vasco que nuestros médicos nuestras médicas nuestros profesionales de investigación declaren que están exentos de conflictos de interés cuando hacen un artículo científico

cuando van a un congreso y hacen una exposición cuando están en una consulta o cuando compran

o cuando compran vacunas los que toman decisiones en el departamento de salud

los investigadores que tenemos en biocruces en biodonosti bioaraba que colaboran con la privada

tienen que firmar en sus conclusiones que están exentos de conflictos de interés con la industria la comisión

los que deciden los tipos de medicamentos tienen que firmar una declaración de interés

no se puede servir a dos amos necesitamos especialmente relaciones éticas con la industria yo no digo

pero hay que decirles que no sean tan ambiciosos en las ganancias en las tasas de ganancias a veces las capacidades de fijar precios de la industria farmacéutica pasan por encima de gobiernos pasan por encima

como la unión europea los lobbies son impresionantes nosotros humildemente desde euskadi somos pocos los vascos y las vascas pero somos buenos vamos a intentar organizar éticamente nuestra profesión allí donde se toman decisiones

tanto en la práctica clínica como en la práctica investigativa o docente

muchas gracias señora presidenta lehendakari consejera consejero señorías

flexibilidad en ese sentido para llegar al acuerdo que hemos alcanzado y también el hecho de que haya traído

momentos además convulsos en la sanidad pública vasca

engrandezcan seguir mejorando la práctica evitar

identifica en alguna medida pues son disfunciones del sistema y

pues se deben ir estudiando y las leyes y las normas deben ir

usted de una manera un poco más reglamentista quería abordar algunas situaciones es posible que el tema

tenemos y en ese sentido está claro que usted señor uria

usted ha identificado dos importantes o graves situaciones entendemos que aquí igual

pero sí que es cierto que habrá situaciones en las que sea necesario mejorar el control

a la prestación de la sanidad y desde luego nosotros

hemos llegado a un acuerdo nosotros planteábamos el hecho de analizar en qué situación está y que se actualicen por parte

de los que usted hablaba en el sistema sanitario público vasco y especialmente lo hablamos en los procesos a

de las que se pueden tratar efectivamente la enmienda que hemos suscrito habla de una cuestión que es una referencia que es el código ético es decir

la señora larrauri sin duda pero velar por ese código ético

de la comunidad autónoma y de su sector público influye en las personas que dependen de esos

las direcciones de las responsables de los cargos públicos dependientes del departamento de sanidad para ver cuántas personas cuelgan de su mandato o de su dirección y en ese sentido entender que esas personas

los funcionarios los técnicos de la administración o los médicos las personas que investigan

de esa supervisión del código ético que afecta a sus jefes o a sus directores

va a haber una buena oportunidad no sé si será usted el ponente seguramente será el señor hernández pero va a tener usted buena oportunidad el de empleo público que se desarrolla ahora que está en trámite

en el parlamento una vez de tocar esa cuestión y precisamente es quizás

de referencia y de relevancia el artículo ciento sesenta y siete de ese proyecto de ley de empleo público en trámite con el código ético

en concreto principios generales que inspiran el código ético y de conducta del personal empleado público vasco donde hace referencia seguidamente a la ley reguladora de la conducta y de los conflictos de intereses de los cargo públicos

de referencia para que sea ese código ético y de conflictos de intereses de los cargos públicos también aplicado

al personal empleado público vasco está claro que la dirección que se pueda recorrer va en lo que usted hay un proyecto de ley nada mejor para fijar ahí determinadas cuestiones que por otra parte

en relación con controlar esa posible mala praxis o esas costumbres desviadas en relación con lo que es una actuación correcta es decir está el código ético conductas de los cargos

estará esa ley de empleo público si el parlamento así la aprueba pero está también el real decreto legislativo cinco barra dos mil

donde habla de las cuestiones que tienen que ver

personal funcionario y laboral en relación con los deberes de los empleados públicos y el artículo cincuenta y dos el artículo cincuenta y tres y el artículo cincuenta y cuatro de ese real decreto legislativo cinco barra dos mil quince

afecta y se puede aplicar perfectamente y habla en sus artículos de los deberes de los empleados públicos en el código de conducta habla de los principios éticos en ese sentido dice entre otros muchos puntos

actividad privada interés que pueda suponer el riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público no contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras ni obligaciones patrimoniales negocios jurídicos

no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada esto dice el artículo cincuenta y tres

que se aplica y que se puede aplicar y que se debe aplicar como el artículo cincuenta y cuatro donde están los principios de conducta donde se dice que entre otras muchas cuestiones que afectan a los empleados públicos que administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad estamos hablando de una cuestión de austeridad también porque efectivamente una mala praxis en eso encarece

y no utilizarán los mismo en provecho propio o personas allegadas y también se dice

favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de usos o de cuestiones habituales en ese sentido

hay posibilidades hay normas que se pueden aplicar y desde luego

que se deben aplicar por parte de la autoridad sanitaria en este caso por parte de los que cumpliendo el código de conducta y ética como altos cargos

a sus subordinados yo leí con interés y seguramente esta iniciativa pueda venir de allí un congreso unas jornadas de la federación de asociaciones de defensa de la sanidad pública

sanitarios para poder limitar el poder de la industria en la negociación de los precios en los medicamentos y así reducir gastos

por eso de las asociaciones de defensa de la sanidad pública de su iniciativa pero lo importante es que hemos alcanzado ese acuerdo en relación con esos tres puntos el primero que

el estricto cumplimiento del código ético en este momento para quiénes deben cumplirlo pero desde luego

a las personas que dependen de esos cargos eso lo pone claramente

en las referencias al objeto del código ético y de conducta cuando dice tanto en su conducta individual alto cargo como en su proyección en la institución u organización de la que forman parte y respeto a la ciudadanía es decir el cumplimiento del código ético es para el alto cargo

hemos hablado de la normativa que se puede aplicar en este momento y de la que se puede

entiendo que su grupo lo tratará de hacer en el trámite legislativo y desde luego hemos aceptado

podía ser de otra manera la propuesta de que esta medida que hablábamos del código ético y

o el parlamento en este caso vuelvo a repetir esta medida afecta al conjunto de los profesionales de osakidetza así como a los que desarrollan su actividad profesional docente investigadora

y asimismo afecta al colectivo de profesionales de plantilla de los institutos de investigación está bien claro

normativa pero estamos sobre la base de que ese

de empleo público puede aquilatar y puede controlar de una manera mucho más eficiente lo que usted nos pide
también desde aquí agradecer al señor uria sobre todo a la señora larrauri por el esfuerzo por llegar a este acuerdo muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

que efectivamente este es un asunto que lo ha traído otras veces de una forma transversal

como usted ha dicho el código ético es una realidad desde hace ya dos legislaturas y efectivamente los profesionales lo firman y lo cumplen porque además entiendo que se lo creen

necesario tomar algunas medidas que exista un mayor control

lo que no podemos apoyar desde el grupo socialista es ese punto de partida de una culpabilidad casi de facto de algunos profesionales en un debate sobre un tema muy parecido le dije que yo entendía que quienes acuden a un congreso que quienes son invitados incluso a quienes se les pagan la asistencia a esos

no creo que lo hagan por intereses que luego tienen que pagar después

entendemos que la ética es algo fundamental que debe de primar entre los profesionales médicos y desde luego también en el ejercicio de la política pero como le digo

y desde luego todo mi voto de confianza para los profesionales que trabajan en la sanidad pública porque además de eso usted sabe mucho y entiendo que usted en el ejercicio de su profesión
nunca ha trabajado incumpliendo nada de eso que hoy denuncia aquí así que nada más y muchas gracias eskerrik asko

eguerdi on guztioi en primer lugar celebrar el acuerdo que hemos alcanzado con el grupo proponente y el otro grupo enmendante y agradecer la flexibilidad que ha mostrado tanto el señor barrio como el señor uria y la señora rojo para poder llegar a un punto de encuentro que nos ha permitido este acuerdo y

y agradecer el esfuerzo por poder llegar a lo esencial a lo que nos une

avanzar en un mayor control en los posibles conflictos de intereses que pueda haber todos y todas

el objetivo del sector público debe ser avanzar en un cambio cultural hacia en un sentido más ético y moral

la ciudadanía siga manteniendo la confianza en lo público insisto siga manteniendo porque entiendo que la ciudadanía percibe el respeto hacia las instituciones públicas vascas y hacia sus profesionales y esto no es el tema de los conflictos de intereses aunque la iniciativa se circunscribe al ámbito sanitario pues

a todo el sector público estamos de acuerdo en

de los conflictos de intereses sin embargo discrepamos sobre la fórmula inicialmente planteada por el proponente que planteaba una declaración previa para todos absolutamente todos y todas las profesionales de estar exentos

entendemos que esta no es la fórmula adecuada porque no procede exigir en todos los casos en los que se nos plantea ni es eficaz entendemos existen multitud de supuestos y de posibles efectos ante la insistencia de un conflicto de intereses pueden que existan

que exista conflicto de intereses y lo necesario sea explicitarlo que el profesional o la profesional explicite qué conflicto de intereses tiene pues el caso de las

clínica como ha nombrado usted señor uria en el que lo deseable es que la profesional o profesional haga informe sobre qué conflicto de intereses tiene para el que lo reciba pueda hacerse su composición del lugar pueda hacerse

de qué influencia pueda haber y así el objetivo en este caso sería una mayor

supondrá unos efectos muchos más restrictivos como puede ser

por lo tanto los supuestos son muy variados y sus efectos también

de estar exento para absolutamente todos sea la fórmula adecuada tampoco es adecuado porque no puede ser una foto fija debe ser un instrumento vivo no nos no puede que una declaración que se haga hoy dentro de un año dentro de

con lo cual tampoco sería eficaz otra cuestión es que entendamos que sea procedente que los profesionales y las profesionales se adhieran a los códigos éticos esa fórmula esa vía sí la vemos

avanzar que se haga un análisis y que se avance en ese mayor control en los supuestos casos de intereses y así lo hemos recogido en la enmienda transaccional en cualquier caso no podemos olvidad como han dicho los portavoces anteriores que ya existe

y conductas públicas y destacar el código que se ha nombrado el código ético y de conducta que el gobierno vasco dispone desde el año dos mil trece documento que ha sufrido evolución adaptándose a las diferentes necesidades por lo tanto

ejerza funciones directivas sometiendo a sus principios valores conductas y modos de actuación con un sistema de evaluación y seguimiento que en el caso de incumplimientos tienen consecuencias por ejemplo pudiendo llegar

siga cumpliendo que se siga exigiendo su cumplimiento y destacar si

que es una previsión que contiene el proyecto de ley de empleo público que hemos recibido en este parlamento para su tramitación y en su caso aprobación que es que todos

al tema de conflicto de ética de códigos éticos

todos los empleados y empleadas públicas se sometan a esos códigos y ahí estaría eso supondría una gran novedad no solo

a todo el personal cuestión que ha sido valorada muy positivamente por expertos de prestigio y por instituciones públicas independientes

sigan avanzando en un mayor control y por último advertir

y respetuosos cuidadosos prudentes en levantar sospechas respecto a los y las profesionales porque

no todas las actuaciones no todas las actuaciones deben ser objeto de sospecha y se debe se les presupone se les debe presuponer una mayor profesionalidad y respeto para que al final

en lo público y sin más agradecer y celebrar el acuerdo y siendo un tema de salud yo sí que quisiera reconocer la labor que ha desempeñado el señor y lamento la injusta persecución interesada que ha sufrido y

lehendakari sailburuak compañeros y compañeras fíjate que

cuatro temas con este asunto de la declaración de estar exentos por parte de los profesionales y las profesionales

y que tiene bastante alcance segundo

y el doctor baselga para intentar demostrar muy brevemente que el asunto al que nos estamos refiriendo es un asunto internacional que afecta a todo el mundo

que se mueven cantidades impensables y que efectivamente

muy complejo de controlar lo tercero intento demostrar que todo el juego de los regalos los congresos los viajes es un juego

condiciona la práctica profesional la práctica investigadora y además he intentado concretar algunos aspectos en donde nuestro gobierno puesto que se va a aprobar esta proposición no de ley puede empezar a

a organizar cómo se organiza la declaración de exentos de interés

he comentado la gente que toma decisiones en el departamento y en osakidetza en las compras de medicamentos y vacunas por ejemplo

no tienen firmado un documento porque documentos de declaración de exentos de interés hay múltiples el mismo tribunal de cuentas tiene un documento

pero esto no es un elemento yo no he traído aquí una discusión administrativa

un asunto de alcance que tiene que ver con la práctica ética ante una situación muy compleja de manejar

ha planteado que como la dimensión del problema es tan amplia

es muy difícil saber a qué nos estamos refiriendo no es difícil saber a qué nos estamos refiriendo es fácil saber a qué nos estamos refiriendo cómo organizar la gestión de la ética en el sector sanitario es difícil pero es fácil de empezar todos los que investigan todas las que investigan firmen un documento que están exentos de conflictos de interés

los miembros de las mesas de contratación para las compras de instrumental y de tecnología en osakidetza

los que toman decisiones sobre la provisión de medicamentos y vacunas

poco a poco el gobierno vasco no tiene capacidad de enfrentarse a las financieras internacionales a la ambición de los consejos de administración de no tenemos capacidad vamos poco a poco en los instrumentos

con los instrumentos que tenemos en nuestra mano no vamos a exigir a todos los médicos de familia que tienen una plaza de trabajo en osakidetza y a todas las profesionales de enfermería firmar un documento

estaba yo de director en un ambulatorio en los años ochenta

cuando me vino una viejecita de ochenta y tantos años

que mi médico no me da esta pastilla qué pastilla es señora

es que yo mire me levanto me la tomo y puedo vivir no me la pueden quitar es un opiáceo es un drama nosotros queremos

tengan claro que no pueden hacer el juego a los consejos de administración de las farmacéuticas no puede ser son muy poderosas

que no es más que el inicio de otras discusiones que vamos a tener ponga en marcha mecanismos operativos no mecanismos

mecanismos operativos donde nuestros investigadores y nuestras investigadoras nuestros médicos y profesionales que toman decisiones

claro decir eso y acabo ya a un congreso de cardiología que junta

todas y todos pagados es un tema bastante complejito

todos y todas pagados es muy complicado manejar eso pero nosotros sí podemos decir a nuestros jefes de servicios de osakidetza que no hagan manifestaciones públicas

si no han firmado antes un documento de que están exentos
conflictos de interés eso es lo que queremos decir esto no es más que el comienzo eskerrik asko uria jauna

visión de vez en cuando apocalíptica que la señora ubera tiene sobre terminados planteamientos hoy le ha tocado a la cuestión que ha planteado

no vale para nada el acuerdo nos mantiene la situación actual solamente ella tiene la fórmula es el cambio cultural en osakidetza o sea

ha decidido pues alejarse de este acuerdo hoy un acuerdo

a que agilice a que analice a que actualice y que ponga negro sobre blanco las cuestiones de las que hoy hemos hablado además

como vasos comunicantes en relación con algunas disfunciones y esto que estábamos planteando y yo creo que no yo creo que y además es que usted lo tiene que saber mejor que yo o igual que yo no sé le digo porque se reitera

y sobre todo muchas veces de cara de la mano

al gobierno pero igual le tengo que decir que igual en la sanidad es donde por lo menos más control

de cuestiones que tienen que ver con las leyes y con su cumplimiento hay muchos más directivos o sea que tienen que velar

pero hay siete sindicatos que operan algunos de ellos implacablemente

sobre la provisión sanitaria sobre el sistema sanitario sobre el personal sanitario médico o sea de una manera

sindical del que usted es absolutamente partidaria militante y además

con una correa de trasmisión bastante comprensible pero todo lo que hemos comentado antes en relación con la normativa en relación con ese código ético y en relación con ese proyecto de ley que estamos viendo como una oportunidad

que no sé si lo llevará usted ese tema o algún compañero o compañera suya pero que vea que haya una oportunidad

es una oportunidad más para avanzar es decir en ese marco de actuación es decir no queremos hacer fatalismo no queremos decir que esto es apocalíptico entendemos que hay problemas pero sí que nos hemos puesto de acuerdo gracias al señor uria

elemento fundamental mire señora ubera es que no se puede decir

un acuerdo sobre el instituto trueba o sobre la educación concertada que no decía nada nuevo

esto sí que dice algo nuevo porque primero identificamos un problema y seguimos avanzando y lo hacemos además el conjunto de los partidos salvo usted que se ha querido marginar en este momento es decir yo creo que hay actuar desde luego con menos capacidad de ver todo tan fatal y todo

bien podría rectificar su posición y aceptar algo que

capaz de controlar y vuelvo a decirlo si usted lleva la ley de empleo público de una manera todavía mucho más efectiva no sé si logrando ese cambio cultural que usted

pero por lo menos de lo que estamos hablando hoy de control de buenas prácticas desde luego

efectivamente como bien decía la señora larrauri o la señora rojo no hay que

la mayoría la inmensa mayoría de quienes tienen que enfrentarse todos los días a la docencia a la investigación a la innovación al tratamiento a la cirugía son gente absolutamente

técnicas y desde luego en su honradez eso vaya por delante y

pero yo rechazo que haya una persecución mire

somos políticos y los responsables políticos y los miembros de un gobierno

están sometidos de una manera intensa como todos los demás o lo estamos a

o bueno a una exigencia en relación con determinadas cuestiones yo desde luego

pero rechazo desde luego que exista ningún tipo de persecución
contra él muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

el acuerdo alcanzado y resaltar el compromiso del gobierno en seguir avanzando en esta materia aunque está claro que los cimientos están puestos y señora ubera si usted quiere y desea

de aprobar o de apoyar la ley de empleo público vasca que ahí lo tenemos recogido estará en sus manos y sin más felicitarme por el acuerdo eskerrik asko